guerra javier de bengoechea estrade juana egibar artola joseba estarrona elizondo josu

larrion ruiz de gauna miren latxaga ugartemendia david

lopez de arroyabe saez de maturana eva lópez de ocariz lópez de munain

tellería orriols luis javier ubera aranzeta rebeka

andueza lorenzo eneko arana varas

barrio baroja carmelo becerra carollo josé ramón

jon iñarritu jon iñarritu luis alejos luis alejos

jon iñarritu alejos luis alejos

luis prudencio alejos zuria jon iñarritu jon

zuria jon iñarritu jon iñarritu

luis alejos luis prudencio alejos

jokin bildarratz jon iñarritu luis alejos luis alejos

luis alejos jon iñarritu jokin bildarratz

jokin bildarratz jon iñarritu zuria zuria luis prudencio alejos

ana isabel otalora ariño begoña

jon alonso aranegui alfonso andueza lorenzo eneko arana varas

barrio baroja carmelo becerra carollo josé ramón berasaluze lazkano irune

julen casanova alonso iker

corcuera leunda susana damborenea basterrechea antonio de andrés guerra javier

urkullu renteria iñigo blanco de angulo eva

larrion ruiz de gauna miren latxaga ugartemendia david

lopez de arroyabe saez de maturana eva lópez de ocariz lópez de munain maría del carmen

zuri zurian luis prudencio alejos

luis alejos zurian zurian

zurian luis alejos luis alejos

nulo bat luis prudencio alejos

zurian zurian luis luis prudencio alejos

zuria zuria luis prudencio alejos antonio rodriguez antonio rodriguez luis prudencio alejos antonio rodriguez antonio rodriguez

luis alejos antonio rodriguez zuria

antonio rodriguez zuria antonio rodriguez

antonio rodriguez luis alejos zuria

zurian antonio rodriguez luis alejos

gracias presidenta los socialistas reconocemos la oportunidad de ese debate aunque

al medir la calidad del sistema educativo en euros dicho desde el respeto reconocemos la oportunidad porque como hemos venido repitiendo en cada ocasión en la que hemos subido a esta tribuna o a otras tribunas

es la garantía de su calidad para todos por eso nos hemos empeñado en las conversaciones con el pnv en que la educación fuera un aspecto central de ese acuerdo

en algunas tertulias por quienes desconocían el contenido de las conversaciones este asunto efectivamente ocupa varias páginas de ese pacto y aquí sí había ya un espacio compartido

entre el resto de los grupos políticos de esta cámara pero no porque hace una semana se hiciera público el informe sino porque aquello que hemos venido a acordar como ejes de actuación de esta legislatura coincidan con los que el resto de los grupos creen que debemos trabajar yo le agradezco a la señora ubera el tono con el que ha hecho su intervención porque

un acuerdo y un gran pacto educativo lo que no compartimos es ese empeño de medir en euros la calidad y nos sorprende que en este y en otros asuntos un partido

que se autodenominan de izquierdas se empecine en cuantificar con euros simplemente

por otros parámetros porque claro que los recursos económicos son muy importantes pero lo es también cómo se administran la eficacia de hecho el propio informe pisa al que se va aludir en repetidas ocasiones en esta tribuna

en lugar de elemento de análisis que es como habría que usarlo para corregir deficiencias indica también por ejemplo

con un gasto mucho menor que la comunidad autónoma vasca tiene unos niveles de eficacia

a la nuestra y priorizar la inversión en educación con la aspiración de alcanzar en un futuro cercano el cinco por ciento del pib es nuestra aspiración también como la de ustedes pero no olvidemos que nuestro sistema educativo

y no se ha visto tan sometido a los recortes que ha sufrido el sistema en el resto de autonomías es decir algo pasa en nuestro sistema educativo

unos resultados tan mediocres por eso nos sorprende que solo se demanden recursos económicos sabemos que la educación no ha de ser entendida como un gasto

irrenunciable además para generar desarrollo económico y bienestar social y sabemos también que invertir en educación es hacerlo en cohesión social y en competitividad es cierto que la educación vasca además tiene unas características propias singulares

tiene una distinta situación sociolingüística de las dos lenguas oficiales el equilibrio entre las redes educativas su potente y continuada atención a necesidades educativas de todo el alumnado desde un planteamiento inclusivo

del entramado educativo vasco pero es también cierto que quizás estos hechos diferenciadores de la estructura educativa vasca han provocado que en algunos momentos nos hayamos abstraído en exceso

alejándonos de las líneas claves del debate que está cogiendo fuerza en el ámbito mundial así que creo que es bueno que hagamos un análisis serio los socialistas veníamos alertando desde hace bastante tiempo sobre algunos déficits de nuestro sistema educativo porque lo apuntaban ya otros informes de evaluación

insistimos en campaña electoral también y hemos conseguido que esta cuestión la necesidad de un nuevo pacto educativo

en la escuela pública como garantía de igualdad pero buscando la equidad debía ser cuestión esencial para la necesaria transformación que requiere nuestro país

es verdad que no es el momento de encontrar excusas a lo que dice o deja de decir el informe

hay que tratar de buscar soluciones y sobre todo tratar de hacer de la necesidad virtud

debiera convertirse en una oportunidad para la reflexión rigurosa y compartida de los centros y para no caer ni en el catastrofismo

de las matemáticas de la comprensión lectora porque con equidad

y sin caer en la falsa idea de que la calidad y la equidad son incompatibles es como encontraremos el camino correcto queremos impulsar un modelo de educación integral

y las humanidades que se complemente con las artes y el deporte y se dote al alumnado de una visión crítica y transformadora de la realidad y este modelo tal y como se expresa la enmienda firmada conjuntamente con el grupo nacionalistas vascos se sustentará

que tendrá que ser obligatoriamente si queremos que sea de verdad un proyecto educativo serio para el país y una ley que dure fruto de un pacto educativo consensuado

otros momentos para plantear determinados debates mejor que este yo lo que sí quiero decirle es que si hay voluntad política por parte de todos los grupos parlamentarios

es el momento y la oportunidad de que el primer gran acuerdo de esta legislatura que ahora comienza sea precisamente poner las bases de ese gran pacto educativo

y sociales los propios centros que tienen mucho que decir

de que cada gobierno y cada partido de turno pone en marcha su propio modelo educativo y jamás hemos sido capaces de hacer una reflexión compartida sobre una parte de nuestro sistema de bienestar social que es la educación que es fundamental y troncal para conseguir tener una sociedad sana
equilibrada y desde luego con perspectivas de futuro muchas gracias eskerrik asko pastor jauna

no vamos a dar la espalda a este debate pero desde luego tenemos claro que no es el único factor

un sistema educativo de calidad y equitativo porque si hablamos de números también podemos ofrecer una gran cantidad de ellas y entendemos que muy positivas para euskadi

es el veintitrés por ciento del total del presupuesto del gobierno el gasto en educación por habitante en euskadi

que dos años antes el gasto corriente ha aumentado el dos coma cuatro por ciento

de esta proposición no de ley que la media en europa de la inversión pública en educación es del cinco por ciento del producto interior bruto mientras que euskadi es del tres coma ocho pero también debería tener en cuenta por ejemplo que el gasto total por alumno en euskadi está por encima de la media europea y de países como francia aunque por debajo de otros como alemania y finlandia

el consejo escolar del estado elabora una estadística para medir el gasto público por alumno de enseñanza no universitaria según la titularidad del centro que con datos de dos mil doce sitúa a euskadi en la primera posición en ambos indicadores seguida de navarra en relación a los presupuestos del área de educación del departamento de educación política lingüística y cultura en el periodo de estudio dos mil trece dos mil quince debe tenerse en cuenta

genera la reordenación departamental y por tanto complica el seguimiento de la evaluación de algunos apartados

este departamento junto con el de salud mantiene un lugar preferente entre el resto en base al porcentaje de presupuesto asignado un veintisiete coma seis por ciento descontando el pago de la deuda además en el ejercicio dos mil catorce

y un cuatro coma setenta y uno por ciento su gasto respecto a dos mil trece y todo esto efectivamente como mencionaba el señor pastor en su intervención ello

que en otras comunidades beraz finantzazioaz luze jardun dezakegu

evaluaciones internas son una herramienta fundamental para la mejora continua de los centros eso lo sabemos todas y todos posibilitan la revisión permanente de nuestros objetivos y programas desde una visión autocrítica y evitando caer en la autocomplacencia las pruebas realizadas por la ofrecen una foto comparada de los diversos sistemas educativos dicho esto no conviene reducir la calidad

la valía de un sistema educativo no puede apoyarse y fundamentarse únicamente en la calificación de tres áreas o disciplinas que únicamente tienen relación con el saber

un fraude para el alumnado y para la sociedad contentarse con la obtención de buenas calificaciones en este sentido únicamente nuestro sistema educativo hace esta apuesta porque considera

para adquirir las capacidades habilidades y herramientas necesarias para ser una persona autónoma en la vida académica

la apuesta que hace nuestro sistema educativo es más arriesgada porque hace una apuesta a futuro una apuesta centrada en la persona y en el desarrollo de la misma

de replantearse la educación así como refrendada por diferentes teóricos de la educación por tanto nuestro sistema educativo vasco debe completar el diseño de su propio sistema de evaluación introduciendo las competencias transversales a las ya evaluadas competencias disciplinarias

será el mejor procedimiento para detectar y avanzar en la calidad de nuestro sistema educativo durante esta última década el sistema educativo en euskadi ha avanzado de manera muy significativa en la progresiva implantación de la cultura de la evaluación

los informes y resultados de las evaluaciones de diagnóstico remitidos a los centros se han convertido en elemento crucial de debate y de reflexión interna en la práctica totalidad de los centros

enseñanza aprendizaje desde la perspectiva de la mejora continua

para completar la ingente información interna de que disponen

bien compararse con otros centros similares al suyo desde el punto de vista socioeconómico o sociocultural modelo lingüístico titularidad

fruto de este exhaustivo proceso de evaluación cada centro ha elaborado y actualizados periódicamente su plan de mejora hemos hablado de esto también

enriquecidos con la aportación tanto de los berritzeguneak como de la inspección y se han adoptado regularmente las acciones de mejora necesarias hemen aipatu diren emaitzak ezagutu

los programas y las medidas puestas en marcha por el gobierno vasco para la mejora no son de efecto inmediato

de diagnóstico de dos mil trece el departamento de educación adoptó una serie de programas a partir del curso dos mil catorce dos mil quince cuyo efecto sabemos que no es inmediato como para que tuvieran efectos en el mes de mayo de dos mil quince

que es el programa de detección y atención temprana de las dificultades de desarrollo y aprendizaje el programa hamaika esku y también el plan de mejora del sistema educativo de euskadi dos mil dieciséis dos mil veinte

esta es una prioridad para el gobierno vasco y para eaj pnv hemos logrado garantizar un nivel de calidad universal pero es evidente que nuestro próximo reto es seguir avanzando en la excelencia hemos asumido compromisos concretos un pacto educativo para una nueva ley vasca de educación un proyecto que va a necesitar amplios consensos en la comunidad educativa y también en el seno de este parlamento eta akordioak erdiesteko

buenos días a todos señoras y señores la verdad es que al principio de estas intervenciones

que estamos ante un tema fundamental uno de los temas más importantes que nos van a ocupar esta legislatura y son fundamentales por dos razones

y segundo por un tema muy importante el lehendakari cuando defendió su candidatura habló de un

que nos une a todos como sociedad para tirar juntos adelante entonces si permitimos que la educación sea por sus resultados

estaremos perdiendo capital social claro ahora nos encontramos en un momento en el que la sociedad

tiene que asumir que sus resultados en educación no son buenos y eso es muy desmoralizante

paso a analizar ahora la proposición no de ley que ha presentado el grupo de bildu le voy a decir lo mismo que le han dicho

el problema que tenemos no es un problema de gasto en nuestra opinión es un problema de modelo

hay que gastar y todos sabemos por ejemplo que en euskadi muchos centros se construyeron en los años ochenta son centros que tienen ya van a tener enseguida cincuenta años

se han desarrollado áreas de nuestros municipios en los que hay que implantar nuevos centros el gasto es muy importante pero el problema que tenemos nosotros aquí no es de gasto es de modelo educativo

tenemos pruebas de ello por ejemplo la comunidad de madrid que gasta lo mismo casi la mitad que nosotros en educación pues se está codeando

japón estonia corea del sur finlandia

prácticamente la mitad que nosotros o sea que vamos a votar que no a su proposición no de ley por esa razón porque creemos que no es un problema de gasto

a lo que es la inversión pero que es un problema de modelo educativo y ustedes no han cuestionado el modelo solo han cuestionado el gasto o por lo menos no lo ha cuestionado como nosotros sí que lo cuestionamos entonces vamos a vamos a volver vamos a ir ahora

el grupo socialista y el grupo nacionalista vasco vamos a ver me temo que tampoco

con ellos por una razón señora consejera y lo siento mucho porque estoy segura de que usted está llena de buena voluntad pero claro hay un dicho que dice que el camino del infierno está pavimentado de buenas voluntades

se ha evaluado el modelo y el modelo ha estado liderado por usted sí sí se ha evaluado el modelo porque otros modelos con mucha menos inversión

con mucha más inversión ha conseguido peores resultados ha entrado en un declive pero además en un declive que es más sangrante porque

es que han progresado han progresado es decir incluso la estabilidad supondría decadencia si todos los que están alrededor de nosotros

sus resultados entonces en nuestra opinión lo que ha fracasado aquí es el modelo y usted lidera ese modelo usted ha sido la que lo ha diseñado sí por ejemplo mire vamos a hablar

del currículum vasco es algo que a nosotros nos parece increíble todas

siete u ocho competencias y llegó usted aquí y dijo que como nosotros somos lo más de lo más pasó de las siete u ocho competencias

en todas las áreas que nos rodean a doce a doce entonces claro eso y usted sabe que me gustaría

lo que decían ustedes sobre ese aumento de competencias en debates anteriores la señora celaá lo que decía ahora no sé si ustedes han cambiado de opinión pero le estoy poniendo por heziberri

cosas tan absurdas como que niños que llevan toda la educación estudiando en euskera porque uno de sus padres no es euskaldun tienen que hacer el examen pisa en castellano

vamos a ver bueno la ocde no sé si lo dirá pero los niños aquí en el país vasco que estudian en euskera

porque puede haber términos como zilbor estea por ejemplo que ellos han estudiado y que si se encuentran

no saben lo que es sigamos tenemos un programa con tenemos un sistema con muchas más deficiencias

tenemos unos planes de formación que tienen que anularse porque no consiguen el cuarenta por ciento mínimo de asistencia pero mire no es el momento ahora de dar ejemplos no es el momento ahora no es momento ahora de dar ejemplos

discutir los ejemplos y lo que tenemos que discutir es el modelo pueden llamarles ustedes sustitución de modelo o reforma integral de modelo

es en nuestra opinión lo que no pueden es traernos aquí y proponernos un pacto por la educación

tendrán que traernos contenido qué plantean en ese pacto de la educación

por la educación están ustedes pidiendo dos cosas o extender la culpa a todos

o más bien lo que nos está pidiendo es una tregua es una tregua

que tenemos urgencia porque dentro de unos días dentro de apenas no llega a qué a dos semanas estaremos diciendo el año que viene

y estamos a quince días de dos mil diecisiete entonces ya estaremos diciendo entonces mire

tenemos que tener esas comisiones pero las comisiones y las ponencias son

pero es que estaremos diciendo dentro de unos días que el año que viene tenemos otra vez la evaluación de pisa y usted

y eso quiere decir que el modelo ha suspendido y eso quiere decir

ese modelo que es usted ha suspendido usted ha suspendido y además ha arrastrado a la comunidad educativa

unos niveles de desmoralización ya le digo podría darle mil ejemplos y ejemplos sacados todos por cierto del informe del consejo escolar de euskadi

son el informe que usted presenta y que usted avala entonces

que lo que necesitamos para resumir es un cambio de modelo o una reforma integral de este modelo y que además creemos

la persona que ha liderado este modelo hasta ahora dudamos de su capacidad para liderar ese cambio porque nos decía la representante del pnv me ha encantado tenemos un reto por delante seguir avanzando en la excelencia que va el reto que seguimos adelante es

la fase de declive ese es el reto que tenemos adelante conseguir que la curva gire hacia arriba no un reto de seguir avanzando en la excelencia qué excelencia voy a decir rápido usted ha dicho muchas cosas y está muy bien que se hagan pero vamos a ver por ejemplo usted ha nombrado el hamaika esku y todas esas cosas que hacemos para hay

para mejorar me parece muy bien pero por ejemplo ustedes han obviado cosas y lo siento porque es un ejemplo

elementales como la detección de la alta capacidad en los alumnados resulta que en los países estadísticamente por nuestra población

alumnos de alta capacidad saben cuántos ha detectado este modelo este sistema

solamente para dar una pincelada pero repito no es el momento de ejemplos esos eran posteriores es el momento de pensar profundamente en una reforma importante del modelo en un cambio

pensar que si la persona que nos ha liderado en el declive es capaz de liderarnos para salir de él que ese es nuestro reto salir del declive

zentro publikoetan ematen dena un sistema público que establece que la educación es obligatoria y gratuita y debe ser

un país donde tampoco se paga por los libros ni por el material escolar y todos los niños reciben una comida caliente al día en el colegio también gratuita en el caso de que el niño viva a más de cinco km se puede organizar el transporte

barne produktu gordinaren ehuneko zortzia un país en el que la educación se considera la llave para el desarrollo y para lo cual se le dota de entre once y un doce por ciento del presupuesto es decir el ocho por ciento del producto interior bruto

estandarizatuetatik aldentzen dira la educación se personaliza desde los primeros cursos se interviene para apoyar

con lo que se evita que sus dificultades aumenten con los años y se minimizan los porcentajes de fracaso escolar se respeta el ritmo de aprendizaje

y se huye de las pruebas y actividades estandarizadas irakasleek ez dituzte hainbeste klase orduak ematen noski

pues no se ha enterado no sé si el pnv le ha informado no le ha informado pero le digo yo y le aviso para que sepa cuál es nuestra voluntad y en qué predisposición nos encontramos

fundazio bat empieza por educar que por cierto irakasleak

porque me ha contestado usted como si yo hubiera dicho que usted no tiene voluntad alguna de acordar y ha sido todo lo contrario le he reconocido que había disposición sí he dicho es verdad y lo sigo manteniendo que su proposición original

del presupuesto de los euros y hacía una mezcla bastante perversa entre euros y calidad educativa y esa ecuación no funciona como usted la quiso dibujar

corregir y yo tampoco he dicho que estemos apostando por un pacto político exclusivamente es más he repetido hasta en tres ocasiones

y que el pacto tiene que ser un pacto político y social con todos los sectores educativos y sociales y con los propios agentes afectados incluso con los centros escolares

si usted estaba oyendo otra cosa distinta pero me quedo con la parte positiva la disposición a intentar llegar a un acuerdo lo que menos me preocupa es con cuánto apoyo

la necesidad y la convicción de que se necesita un gran pacto educativo señora bengoechea un gran pacto educativo usted sinceramente perdone que le diga pero no es el pp el partido más indicado para dar lecciones

ni sobre pactos educativos porque ustedes han hecho un rodillo laminador

y se cargaron el único intento serio que ha habido en este país de hacer un gran pacto educativo con el señor gabilondo

minuto por lo tanto pónganse ahora a ello y hagamos de verdad esa tarea entre todos los grupos parlamentarios y entre los agentes sociales y todos los colectivos claro que sí porque es así como tiene garantía de futuro y de funcionamiento y en fin a mí me gustaría

sinceramente se lo digo con respecto me parece que usted hablaba aquí un poco de oídas es decir hacer un relato de lo que ocurre en finlandia en el país de las maravillas y tal pues es muy fácil se coge uno la enciclopedia o cualquier manual de educación

fantástica pero después a mí me gustaría haber oído y no lo he oído cuáles son sus propuestas las de podemos

y sobre el tema concreto que nos afecta que es la mejora de nuestro sistema educativo en este concreto porque

ni ningún otro modelo evalúa competencias

lingüísticas académicas científicas de compresión lectora no el modelo educativo concreto podemos discutir por supuesto también sobre el modelo educativo vasco yo también he dicho que probablemente esa especie de autosatisfacción con la que recurrentemente hemos observado nuestra realidad educativa pues nos ha podido hacer caer en determinados momentos una cierta autocomplacencia y eso te evita tener una mirada crítica sobre lo que está pasando

es para que nos pongamos todos las pilas y empecemos a pensar que por ser vascos

pero sí tenemos afortunadamente más recursos en esta sociedad que tienen otras de nuestro entorno y tenemos que aprovecharlas y rentabilizarlas al máximo para ser capaces de poner en marcha ahora sí de verdad un modelo educativo en el que se puedan mirar otros países de europa como ahora hacemos todos en finlandia al que se refería

eskerrik asko mahi buru andrea señora bengoechea me he creído por un momento que en vez de en un pleno ordinario estábamos en un pleno de control le ha interpelado usted directamente a la consejera y

centrarme en tres de ellas que estoy segura que la consejera uriarte compartirá conmigo en primer lugar no es euskadi quien decide en qué idioma se hacen los exámenes pisa es el propio

poder después evaluar y hacer las comparativas por tanto no es cierto que

quien lo establezca también ha suspendido usted a la consejera y su modelo y heziberri dice que ha sido evaluado por pisa y que ha sido suspendido no es así el modelo

heziberri heziberri simplemente en el año dos mil quince que es el mismo año en el que

el modelo que se ha evaluado desde luego no es heziberri es el anterior

también ha hablado usted del modelo basado en competencias también ha hablado de la unesco se ha hablado varios de los intervinientes también han hecho mención a la unesco y es que

avala ese modelo basado en competencias aunque puede ser que pues también vaya por un mal camino y por último también me gustaría decirle

que respecto al pacto al pacto de educación al pacto para una nueva ley que qué objetivo tiene que no tiene contenidos es que precisamente

un libro abierto donde todos y todas la comunidad educativa todos los agentes podamos aportar

y no había margen de maniobra por tanto yo creo que en nombre de la consejera

estas tres respuestas se merecía señora bengoechea hobekuntzarako tartea autokritika

ebaluatzeko insistimos en la necesidad de seguir desarrollando planes de mejora de acuerdo a las líneas estratégicas establecidas en el modelo educativo pedagógico impulsando programas para mejorar la compresión lectora y la competencia matemática y científica de esta manera se pretende reducir el número

y aumentar el porcentaje de los situados en los niveles más elevados tal y como quedó reflejado expresamente en el acuerdo suscrito recientemente en el marco de la configuración del nuevo

a las réplicas y hay algunas que no se pueden dejar de decir vamos a ver si estamos hablando de educación

actual de la urgencia y de la premura yo me veo obligada a dirigirme a la consejera por una razón usted dice

el modelo yo no sé pero le voy a poner un ejemplo claro hay tres hospitales

y más o menos con el mismo tipo de enfermos

y usted me va a decir que cuando se va a hacer un análisis comparativo se va a decir no no aquí solo estamos evaluando la salud de los enfermos no no perdón

el tipo de hospital y qué liderazgo tiene o sea que sí evaluar a los estudiantes es evaluar el modelo el modelo es evaluar a los líderes de ese modelo eso para mí queda claro luego

ustedes han pasado grandes tiempos en la legislatura pasada

perfecto pero sabe qué resulta que las autonomías en españa

y las que han sido gobernadas por el partido popular esa es una obviedad ha mejorado galicia

bueno vamos a ver entonces lo que sí quiero terminar y me hubiera gustado terminar dirigiéndome al lehendakari porque vale no es una sesión

tampoco en este tema yo voy a hablar de pájaros y flores quiero decirle una cosa muy clara

quiero decirle una cosa muy clara no hay un grupo en esta cámara más deseoso en un pacto por la educación tenemos un problema y es que nosotros tenemos un pacto previo y es un pacto previo con los ciudadanos

a continuación no pueden traicionar ese primero entonces siendo el grupo que más desea un pacto por la educación

dado que ustedes proponen porque ustedes no son animadores socioculturales ustedes proponen no van a las escuelas como los animadores socioculturales

ustedes proponen entonces antes de dar un cheque en blanco necesitamos conocer orientaciones caminos porque ya le digo comuníqueselo al lehendakari por favor

pero por no traicionar el que ya tenemos con los ciudadanos no podemos

ni dar treguas y seguimos con la duda y lo siento mucho si el equipo

que nos han llevado a esta situación es el equipo y el liderazgo que nos puede sacar de ello estamos preocupados porque aquí el tiempo pasa muy fácil pero es que ocho años con un mismo liderazgo

a los diez años y llegar hasta los dieciocho es decir su vida formativa más intensa

el tempo de la ponencia el tempo de no sé qué para un niño

y en las etapas más importantes entonces nos ratificamos en que nadie

queremos saber hacia dónde se va qué se quiere hacer y cómo se va a lograr de acuerdo y sobre todo lo siento mucho

la capacidad del liderazgo del equipo que actualmente nos ha llevado a este declive muchas gracias eskerrik asko bengoechea andrea eskertzen da

extraren erdia ere kobratu hace unos años

pero descubrieron que los resultados eran mejores si se cedía más poder a la autonomía de los colegios una demanda antigua de los centros de enseñanza vascos los centros deben de tener autonomía para poderse gestionar dependiendo de la realidad de cada zona beste

intentar atajar los problemas de orden académico en los primeros años de escolarización es la mejor solución para evitar problemas mayores

y que más éxito nos va a atraer hala eta guztiz ere cuando las clases

de estos chicos que van más atrasados en finlandia lo que se utiliza

un tutor personal que proporciona clases de apoyo y según los diferentes niveles de necesidad figura hori ere gure

y como le decía señor pastor es importante también cuantificar en presupuestos es fundamental

sarrera gehiago siguiendo con el ejemplo finlandés cada colegio tiene su autonomía para poder organizar su programa de estudios es una de las propuestas que nosotros tenemos en nuestro programa la autonomía de los centros la autonomía de los colegios que enmarca dentro de un sistema

se concibe como algo gratuito e igual para todos en finlandia

los niños tienen acceso a centros de enseñanza similares y no pagan por el material los colegios proporcionan libros ordenadores

educativa es consensuada entre los profesores y los alumnos esto es lo que deberíamos llamar un pacto educativo incluyendo a las familias

necesitamos que la educación sea un tema sobre el que exista consenso político respecto a su importancia lo que supone en el sistema educativo que permite que este se desarrolle completamente y pueda proporcionar y madurar dentro de los mismos parámetros de los que hablaba equidad participación e igualdad beste aldetik eajri esango nioke

euskal eskola publikoa indartzeko y lo que le quería comentar a la señora bengoechea ustedes dicen que el problema

claro el modelo pero qué hablan de privatizar la educación ese es el modelo que ustedes proponen habría que hacer también una reflexión profunda

jaun andreok egun on guztioi me estreno ante este parlamento

para defender una necesaria proposición no de ley relativa al comportamiento de las personas que ocupan altos cargos en las administraciones vascas

y del fenómeno de las llamadas puertas giratorias mi presencia en esta cámara al igual que la del resto de integrantes de elkarrekin no es fruto de la casualidad

y menos aún hacerlo con la fuerza que las urnas nos dieron el pasado veinticinco de septiembre

y de quiénes la ejercen y lo ha hecho a peor desde luego

una parte de esta sociedad ha dejado de creer en su clase política tradicional podremos debatir si esa pérdida de confianza es justa o es injustificada si es puntual

o si a ello han podido ayudar los episodios de clientelismo y tráfico de influencias que también se han producido en euskadi pero créanme una parte importante de la sociedad vasca ya no pone la mano en el fuego por sus representantes políticos ni por las instituciones donde estos gobiernan y acaso les parecerá extraño pero a la gente de elkarrekin también nos preocupa el alejamiento de la ciudadanía respecto de la democracia y las instituciones

movidos por intereses particulares y no impulsados por la defensa del interés general y esta preocupación también está en la calle

es cierto que en materia de transparencia en dos mil catorce euskadi lideraba junto con cataluña y castilla y león el ranking de las comunidades autónomas del estado elaborado por la organización transparencia internacional

que al igual que sucede en muchos otros ámbitos compararnos con españa no es un mérito sino un consuelo porque en el ranking internacional de percepción de la corrupción españa está muy pero que muy alejada de los países europeos más desarrollados y prósperos como por otra parte

porque además la transparencia es un concepto tan abstracto como indefinido que no puede reducirse a la mera publicidad de los documentos administrativos como se ha tratado hasta ahora

hacerlo también contra los conflictos de intereses de las personas que ocupan los altos cargos y en última instancia contra su consecuencia más lacerante ese trasvase entre política y empresa privada al que se ha denominado las puertas giratorias

no es tanto si deben existir o no sino en qué situaciones son admisibles a la vista de las consecuencias de tipo ético deontológico y sobre todo a las consecuencias legales que conllevan las decisiones adoptadas por los altos cargos involucrados

establecer un estricto sistema de incompatibilidades dos

tres fiscalizar los posibles conflictos de intereses cuatro hacerlos públicos

desde dos mil catorce euskadi ya dispone de una ley reguladora del código de conducta y de los conflictos de intereses de los cargos públicos que apunta en el sentido que acabo de señalar

por su parte y en virtud de nuestro peculiar entramado jurídico las tres administraciones forales también disponen de sus propios registros de actividades y de bienes y derechos patrimoniales centrados en este caso en regular las obligaciones de sus propios altos cargos y por último tenemos las administraciones locales sujetas con carácter general a la legislación básica estatal de régimen local

en su caso pudiera aprobar cada municipio sin embargo nuestro grupo considera que esta dispersión de registros de actividades e intereses

es una situación que en ningún caso facilita la adecuada fiscalización

por eso hoy y aquí proponemos que se constituya una agencia vasca de transparencia tal y como se establecía en el proyecto de ley de transparencia participación ciudadana y buen gobierno

autónoma y plenamente independiente del resto de poderes es la pieza angular necesaria para revestir de credibilidad al fragmentado panorama normativo vasco en esta materia con el debido soporte legal debemos ser capaces de conferir a dicha agencia la competencia para coordinar los diferentes registros existentes en el país

residenciar en ella el régimen sancionador y establecer igualmente

la información que precise para el ejercicio de sus funciones dar este paso es para euskadi la diferencia entre aprobar raspado o avanzar hacia la excelencia

nuestra propuesta de poner en marcha un registro público que permita visibilizar la labor de los lobbies en la política vasca porque también los hay en consecuencia con el trabajo que se está realizando en el ámbito europeo

hasta aquí llegan los compromisos que en los últimos días hemos conseguido consensuar con la mayoría de los grupos políticos de este parlamento y que les ha sido entregado recientemente desde el día de nuestro estreno en elkarrekin podemos dejamos clara nuestra apuesta por construir un país mejor

un país más justo y más sostenible creemos que llegar a un pacto sobre la transparencia es un paso más en esta dirección e invitamos al conjunto de la cámara a que lo apoye como tal

sin embargo en nuestro grupo no nos conformamos con este avance de modo que a lo largo de toda la legislatura seguiremos trabajando por mejorar el marco legalmente vigente en esta materia

así por ejemplo el pasado veintiséis de noviembre entró en vigor el decreto ciento cincuenta y seis barra dos mil dieciséis

este decreto llega con casi tres años de retraso y es de aplicación únicamente en el ámbito autonómico pero en cualquier caso bienvenido sea ese decreto asigna al servicio de registro de personal de la dirección de función pública del gobierno vasco las funciones de custodia y fiscalización de las declaraciones presentadas por los altos cargos

ahora bien desde elkarrekin consideramos necesario que el pronunciamiento sobre la compatibilidad o no de las actividades privadas de un alto cargo

independiente del poder ejecutivo que propició el nombramiento de ese alto cargo

y ese ente debería ser la agencia vasca de transparencia porque en materia de transparencia

la credibilidad lo es todo por otra parte la mencionada ley de dos mil catorce establece que en lo referente a conflictos de intereses de las personas que ocupan cargos públicos las obligaciones y cautelas se extiendan desde los dos años anteriores al nombramiento

sin embargo en el decreto real recientemente aprobado

pueda percibir una compensación económica por tal motivo durante un máximo de dos años como pueden imaginar nos resulta poco comprensible por no decir inaceptable que con dinero público la ley permita conceder una suerte de cesantía encubierta para sortear dicha prohibición legal

esperamos y confiamos que este gobierno pueda enmendar en breve esa cuestión en particular en aras de avanzar hacia un marco legal consistente y sobre todo creíble en cualquier caso desde elkarrekin no somos partidarios de limitar de forma arbitraria la trayectoria profesional de ninguna persona que ocupe un alto cargo al contrario preferimos fijar de ante mano con claridad los límites que dicha persona deberá respetar a partir de su paso por la vida pública

al cese sino más allá para que pueda orientar su actividad laboral sin riesgo de contravenir el marco legal por eso nos gustaría que también de cara al futuro la ley establezca la obligatoriedad de que esas personas sigan informando a cerca de sus ocupaciones de carácter profesional durante los diez años siguientes

lamentamos por último la oportunidad perdida por la recientemente aprobada ley de instituciones locales de euskadi para ampliar de forma expresa las exigencias de transparencia

esa exigencia ética y legal en el ámbito municipal resulta de especial importancia en un territorio como euskadi a lo largo y ancho del cual existen decenas de entes y sociedades públicas que a pesar de gestionar recursos también públicos

lo que dificulta el necesario control de su actividad y permite prácticas nada proclives

de sus altos cargos en el fondo de todo este debate subyace el hecho de que las personas que ocupan altos cargos tienen además de una evidente responsabilidad legal una responsabilidad política y pública innegable que hasta ahora

exonera de cualquier otra obligación cuando un responsable público incurre en conductas moralmente reprobables derivadas del ejercicio de su actividad

porque en última instancia la dignidad misma de la institución está directamente vinculada con un cumplimiento íntegro ejemplar honesto y responsable de sus funciones por parte del alto cargo que la representa la corrupción

el amiguismo y las puertas giratorias son comportamientos incompatibles con los fundamentos de la democracia y diría más son de forma indirecta

por eso para terminar animo desde aquí a todas las fuerzas políticas presentes en esta cámara que apoyen esta proposición no de ley transaccional es preciso que nos dotemos de las reglas más robustas creíbles y avanzadas en esta materia es el momento de dejar atrás el aprobado

egun on guztioi yo también intervengo por primera vez mi grupo no es la primera vez que está en esta cámara verdad intervengo para debatir una proposición de ley que realizan ustedes como grupo que ha entrado en la cámara pero que no es la primera vez que se trata en este arco

y que hace referencia como usted muy bien ha dicho a la adopción de medidas de transparencia y de prevención de la corrupción

que está de acuerdo con el planteamiento y la adopción de medidas que garanticen estos objetivos y no solo con palabras

tengo por costumbre revisar antecedentes y se que algunos de ustedes ya la han oído pero como otros llegamos nuevos creo que es conveniente repetirlo porque los socialistas fuimos los primeros y los promotores de irekia de open data del perfil del contratante

estábamos y estamos convencidos de la necesidad de la transparencia en la gestión de lo público porque creemos de verdad en la necesidad de una transparencia radical como un principio básico del funcionamiento para el futuro porque los ciudadanos exigimos más a las administraciones públicas y no comparto eso que ha dicho de que la transparencia es un concepto

y lógicamente es también control de la gestión de los cargos públicos

adecuada clara rigurosa transparente que apueste por la evaluación de las políticas públicas es uno de los puntos de consenso en el acuerdo firmado entre el partido socialista y el partido nacionalista vasco y en el que seguramente estoy convencida coincidimos todos los grupos de esta cámara

de una mejor regulación del ejercicio de la política que además de abrir las puertas a la información y a la participación garantice la eficacia y la dedicación a las funciones públicas de los cargos públicos evitando toda actividad o todo interés que pueda comprometer la imparcialidad de estos en el ejercicio de sus funciones por ello

fuimos los primeros que a falta de un cuerpo legal específico adoptamos un compromiso político el primer código ético de este país ese vacío legal es cierto fue suplido posteriormente por este parlamento con la aprobación consensuada por todas las fuerzas políticas de la ley uno barra dos mil catorce que regula el código de conducta

con más controles pero sin que ello suponga poner vallas al ejercicio de la política por parte de cualquier ciudadano y usted ha dicho de regular

y yo creo que no hay que limitar la trayectoria de un profesional que viene y se compromete con la gestión de lo público desde su experiencia y desde su profesión tiene que poder entrar y salir en dignas condiciones es un camino que como ven ustedes no comienza hoy pero al que le queda un camino por recorrer y un camino que creo hemos reflejado en la enmienda que hemos transaccionado entre el grupo proponente el grupo nacionalista

y a la que yo también espero se sumen el resto de grupos de esta cámara es un camino en el que yo veo tres necesidades fundamentalmente una necesidad de dotarnos de una ley de transparencia de participación ciudadana y buen gobierno del sector público que regule en su articulado y tiempo tendremos de discutir en ese momento

que sí ha de funcionar lógicamente de una forma autónoma e independiente y que ahí nos vamos a encontrar y que regule un registro de lobbies

del cumplimiento de las obligaciones de los cargos públicos de la administración pública vasca por parte del servicio

enmienda transaccional y también creemos en la necesidad de que el gobierno vasco

esta es una propuesta usted me dice seguiremos dando pasos bienvenidos al camino que estamos dando pasos o en el que ya nos encontramos otros desde hace tiempo bienvenidos pónganse al lado nuestro y seguro que avanzaremos todos en transparencia y en mejora

de la democracia entonces creemos que el gobierno vasco tiene que seguir adoptando más allá del mandato que le hace este parlamento medidas que fomenten la transparencia como un instrumento eficaz de prevención

a un uso incorrecto de los recursos públicos yo estoy convencida segura de que esta melodía que escuchan no les desentona a ninguno de los parlamentarios que están hoy aquí sentados y que solo tenemos que ser capaces de ponerle una letra consensuada entre todos

es en el camino en el que tenemos que estar y es el camino en el que nos piden que continuemos los

eta orain goazen harira en su informe del dos mil quince contra la corrupción un organismo ajeno a las instituciones vascas como es transparencia internacional españa

las instituciones vascas en su conjunto sobresalen por su transparencia

si las comparamos como ha dicho el señor becerra con otras entidades del resto de las comunidades autónomas del estado por tanto desde mi grupo y en la parte que nos toca como euzko abertzaleak podemos afirmar con orgullo que compartimos la reflexión del que fuera secretario general de la onu

cuando decía que un gobierno transparente responsable confiable y eficaz

es la base de un desarrollo sostenible y no el resultado de este

con un marco de referencia que diese respuesta a una de las principales exigencias de una sociedad democrática avanzada consolidada esto es la transparencia de la actividad de los poderes públicos y el acceso a la información que obra en su poder como manifestación inequívoca del compromiso

el gobierno vasco remitió en noviembre de dos mil quince

participación ciudadana y buen gobierno este proyecto de ley tenía como misión completar el marco normativo impuesto por la legislación básica estatal

en lo relativo al ámbito de la buena administración y el gobierno abierto lege proiektu honen

con todo esto quiero decir que la disposición del gobierno y de este grupo parlamentario para buscar y encontrar en esta materia el entendimiento y el diálogo ha sido

todo esto quedará para los historiadores porque lamentablemente hay que hablar de este proyecto de ley en pasado a pesar de que en su momento todos los grupos parlamentarios mostraran su disposición a dar el máximo impulso a la tramitación de este proyecto de ley me temo

no evidenciaron esa predisposición como digo queda para los historiadores no contamos con una ley que sin duda era reflejo de avance y modernidad

sino que venía a ajustar su aplicabilidad al resto de niveles institucionales

a los efectos de completar el esquema de buen gobierno en las demás

incluyendo señor becerra tanto las forales como las locales al parecer al parecer lo mollar de esta proposición no de ley y de la ley que voy a tener

la agencia vasca de la transparencia pues bien tengo que decir que de haberse impuesto entonces el espíritu

nos ilumina hoy aquí este órgano también sería hoy una realidad nuestro grupo siempre ha puesto

por qué porque hemos de poder ofrecer a la ciudadanía vasca

de la comunidad autónoma para resolver las reclamaciones que nos pueden plantear contra las resoluciones administrativas que les denieguen el acceso a esa información pública

es para euzko abertzaleak inasumible ya que de no existir este organismo

serían resueltas bien en la jurisdicción contenciosa

por el consejo de transparencia y buen gobierno estatal siempre que se suscribiera un convenio con la administración general del estado por lo que en nuestra comunidad autónoma habría de sufragar los gastos derivados de esa hipotética asunción de competencias

la enmienda transaccional como se ha dicho aquí como ha dicho la señora castelo como ha dicho el señor becerra

de este parlamento el veintiséis de julio del dos mil catorce reguladora

que persigue evitar toda actividad o interés que pudiera comprometer la independencia e imparcialidad de los cargos públicos

un sistema de incompatibilidades y garantías para la imparcialidad en el ejercicio de las funciones públicas hori dela eta eusko jaurlaritzari eskatzen zaiona zera da

interés general pasa por entender la importancia que tiene la transparencia

para la consecución de una sociedad verdaderamente democrática

la transparencia no es un fin en sí mismo sino que ha de servir como herramienta de control del poder esta herramienta solo es efectiva cuando la ciudadanía tiene a su alcance los instrumentos necesarios para conocer cómo

cómo se utilizan los fondos públicos cuál es la actividad pública y política de nuestras instituciones

es por ello que la publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública se revela como los dos pilares básicos de la transparencia

a la administración pública a poner a disposición de la sociedad la información pública de que dispone y que cualquiera a título individual tenga derecho a lograr esa información como he dicho antes en euskera es preciso que en años venideros alumbremos entre todos

una nueva cultura administrativa basada en diversos aspectos relacionados con la buena gobernanza abordada desde el triangulo conceptual que conforman la evaluación de políticas públicas la transparencia y la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos partiendo de la premisa de que ninguno puede funcionar o sostenerse por sí solo

como dice la transaccional sería enormemente positivo que todos los agentes implicados nos comprometiéramos a sacar adelante una ley de estas características lo antes posible

nos lo va a agradecer ya que la transparencia fomenta la responsabilidad compartida entre estas y las instituciones públicas y al mismo tiempo

fomenta la eficacia fomenta la eficiencia la responsabilidad y la cercanía

azkenengoz barrosoren kasua adibidez el fenómeno de las puertas giratorias puede resultar algunas veces más sutil diríamos

deja de ser sospechoso a la vez que escandaloso el paso de algunos demasiados cargos públicos a los consejos de administración o a los órganos de dirección de grandes empresas como puede ser

y ministros varios como solves salgado acebes o rato a telefónica gas natural endesa iberdrola bankia o en nuestro entorno más cercano

o la utilización de la manera más que descarada del entramado de empresas públicas para colocar a los afines y ejemplos de estos

dos exalcalde de leioa en metro de bilbao o exconcejal de ortuella

muchísimos más como ya he dicho por lo tanto no nos puede sorprender que la sociedad esté más que harta de todos estos manejos chanchullos

sometido a las arcas públicas para luego venir a decirnos sin rubor ninguno a pedir a la ciudadanía que toca apretarse el cinturón porque todos y todas

la obligación de poner la transparencia el buen gobierno y la exigencia de honradez de los cargos públicos como máximas de la acción pública

no hay cabida para las medias tintas ante el saqueo de las arcas públicas no hay espacio para las tibiezas ante el uso interesado de la posición que da un cargo público no hay sitio para las justificaciones partidarias por eso

es necesario hablar con claridad de corrupción de puertas giratorias de cómo algunos han dilapidado y dilapidan el dinero público como si no tuviera fin

si hablamos de transparencia seamos transparentes y llamemos a las cosas

porque a pesar de ciertos discursos adanistas en esta cámara y nos pasará a lo largo de esta legislatura no es malo pero conviene recordarlo a lo largo de esta legislatura vamos a repetir

fue precedido de un trabajo intenso también en comisión y en ponencia parlamentaria y hubo también debates importantes en esta cámara

sino que como es lógico y razonable estos parlamentarios no solo los nuevos sino los que también repetimos ya hemos debatido sobre esto y además tenemos también una posición

algunas materias y en esta especialmente compartimos todos la voluntad de recuperar algo que probablemente sea un intangible pero que es una realidad y es que hay una desafección ciudadana

pero en general hacia las instituciones y hacia el ejercicio de la política como tal fruto de esa desafección también

determinadas expresiones que a mi juicio son injustas esto de las puertas giratorias políticos que aprovechan el ejercicio de la política o cuando salen para beneficiarse y pongámosle diez años y bueno pues subamos la apuesta a veinte

el propio ejercicio de la política incluso provocando también que gente con capacidad con formación gente que tiene que aportar mucho y que podría aportar mucho al propio ejercicio de la política

a las penurias o a las dificultades que el propio ejercicio de la política tiene y todos los que estamos aquí lo sabemos

señor becerra hay que recordarlo podríamos también abundar nosotros

y creo que también estamos en esta cámara para aportar algo de serenidad en este tipo de debates y es verdad que la transparencia es una de las

en los últimos años hemos pasado o se ha producido mejor dicho la tormenta perfecta de la transparencia fruto de muchas circunstancias

o malas actitudes o actitudes absolutamente reprobables por parte de funcionarios públicos de cargos electos de partidos políticos esa tormenta de la transparencia ha puesto

primera línea del debate político qué hacemos

para eliminar esa desafección y para recuperar la confianza al menos la confianza o la credibilidad de las instituciones por parte de los ciudadanos y esto es un debate de primer orden aquí nadie está a

que en este parlamento también hemos debatido sobre esto no es menos cierto también que contamos con una legislación básica es verdad con un congreso de los diputados

de transparencia y buen gobierno y conviene recordarlo que supuso un hito legislativo en españa y que ha introducido herramientas útiles para avanzar en esa recuperación de esa confianza que no basta solo con la legislación esto creo que lo compartimos todos

y hace falta del esfuerzo de todos y cada uno de los que nos dedicamos a la política para que con nuestro ejemplo con nuestra actitud con nuestro trabajo también añadamos a lo que dicen las leyes negro sobre blanco esa recuperación del prestigio en el ejercicio de la política

y esto es el marco en el que nos movíamos la pasada legislatura que provocó que el gobierno vasco señor latxaga presentara un proyecto de ley en esta cámara que como usted

cuando alguien es incapaz de acordar pues las responsabilidades suelen ser compartidas no diré yo que la responsabilidad exclusiva

lo que sí es cierto es que en esta prelación de responsabilidades quien tiene la mayor responsabilidad en el impulso legislativo la aprobación de leyes de dotarnos de un marco legislativo es el gobierno vasco y fue incapaz

el gobierno vasco fue incapaz de suscitar los acuerdo suficientes para

torpeza en la búsqueda de consenso por parte del gobierno vasco

enmiendas a la totalidad y nosotros el partido popular presentó más de doscientos cincuenta enmiendas parciales creyendo que teníamos

argumentos más que suficientes para presentar una enmienda a la totalidad preferimos en su momento y esto lo recordé yo en esta tribuna

no pudo ser en aquel momento y esperamos que el gobierno vasco rectifique creemos que está en esa onda

y que esta legislatura tendremos una ley de transparencia no nos vale cualquier ley de transparencia y abriremos y habrá un debate importante e interesante seguro en los próximos meses

a aprobar esto y a acabar con los males de la humanidad permítanme la ironía por lo tanto

los argumentos todos los tenemos sabemos qué compartimos y habrá elementos de discrepancia sin duda

y eso no etiquetará a unos como quienes no quieren la transparencia a mí por ejemplo el debate de las puertas giratorias en demasiadas ocasiones

creo que tenemos que acertar y hacerlo bien creo que la regulación de los lobbies merece por ejemplo y esto es una opinión muy particular merece una ley específica

respondiendo a una realidad social y a una realidad política a la que nos enfrentamos los partidos políticos tenemos el monopolio de la representación pública

en los países de nuestro entorno pero hay una nueva realidad social hay grupos organizados empresariales del tercer sector de toda índole que quieren influir en el legislador esa influencia no tiene porqué ser mala nos dota de herramientas

la redacción de una ley nos dota de información nos da más herramientas valga la redundancia para afrontar mejor la redacción de una ley los grupos de interés no son algo malo per se

poco éticas pueden ser irregulares y calificadas como delictivas y por eso hace falta también transparencia nosotros lo que nos proponemos

ante ustedes es que presentaremos una proposición de ley para que exista una ley específica sobre los grupos de interés que nos parece bien nos parece útil que

solicitándoles en relación con el voto que podamos votar por puntos

lo votaríamos a favor insistiendo en que el plazo más breve posible debe de convertirse ya nos hubiese gustado que hubiera puesto ya pero bueno entendemos que en los acuerdos pasan estas cosas y no

rápidamente los usos que yo considero que son más protocolarios pero poco aportan esto de que instemos al gobierno vasco a que potencie las funciones de la ley hombre va de suyo no

los requerimientos de la ley pero entiendo que usted ha tenido que aceptar esto de la vieja política

del acuerdo poco revolucionario pero entiendo que es más práctico que otra cosa

este de instar al gobierno vasco a que continúe adoptando medidas es decir que siga haciéndolo igual de bien pues bueno

un poco más exigentes vamos a pedir que este proyecto de ley sea remitido a la cámara cuanto antes es decir

pero para mostrar nuestra voluntad de colaboración y de acuerdo votaremos a favor de él si es que tienen ustedes a bien aceptar el voto por puntos votaremos a favor del primer punto y nos abstendremos
en los dos siguientes muchas gracias señora presidenta eskerrik asko sémper jauna

en primer lugar ver que todos los grupos de la cámara están a favor de la transparencia que todos dicen haber hecho mucho pero

famosa ley y no han llegado ustedes a acuerdos con lo cual entiendo que toda esa prioridad no es tal sino en parte un mero postureo que al final acaba revirtiendo en que una ley de transparencia vaya a tener que entrar por tercera vez sin que haya sucedido hasta ahora nada

es cierto que la corrupción es un asunto fundamental la transparencia es un asunto fundamental

han presentado alguna iniciativa ustedes sobre los grupos de interés y los lobbies alguna solicitud para que se cree ese registro

nos invita a hacer una ley en ese sentido pero ha tenido que llegar elkarrekin podemos para hacer esa propuesta

es cierto que las buenas voluntades que muestran todos los grupos aquí se tienen que concretar en algo y quisiera decirle al señor latxaga

la buena voluntad que ahora muestra su grupo transaccionando con nosotros esta propuesta se tiene que convertir en que la ley de transparencia

espero que de forma definitiva a este parlamento para poder ser aprobada

el ejercicio de elegancia no exenta de firmeza que ha hecho con esta propuesta

porque desde luego en elkarrekin podemos vamos a estar vigilantes durante toda la legislatura no solamente para que esa

sino para controlar todos y cada uno de los movimientos que va a hacer el gobierno porque la falta de transparencia es cierto que no provoca la corrupción pero la propicia y que existe en este país una corrupción de baja intensidad llamada clientelismo llamada amiguismo que yo diría que es incluso más nociva que la propia corrupción porque si bien no afecta al código penal

rechaza buena parte de los modos de la política tradicional

y que los socialistas han sido los primeros en hablar de transparencia bueno yo no sé si han sido ustedes los primeros si ha sido el señor sémper si ha sido eh bildu

pero la realidad es que usted ha hablado de transparencia radical de gobierno abierto de buena administración van a tener cuatro años señora castelo ustedes y los señores del pnv para demostrarnos cuál es el grado de transparencia radical

en todas y cada una de las iniciativas que presentemos aquí la oposición ahí nos veremos pinedo andrea

bozketa garaian gardentasunaren aldeko zuen jarrera adierazteko y sí efectivamente señor sémper vamos a permitirles a los grupos

creemos que tienen derecho a esa oportunidad pero no porque consideremos que los dos últimos párrafos han sido necesariamente una cesión de nuestro grupo he hecho un discurso que ha tratado como he dicho antes de ser elegante pero también firme

el contenido de este acuerdo transaccionado con una cesión al gobierno gratuita parece a veces que en su grupo cada vez que oyen la palabra puertas giratorios o control de cargos públicos

vaguen como alma en pena por los juzgados de este país arrastrando esa condena que muchas veces no les llega porque también tienen una justicia a veces

actúen como se está actuando en las juntas generales de bizkaia donde su portavoz javier ruiz está presentando

y por lo tanto les pido que apoyen esta iniciativa por coherencia con lo que están haciendo en otras instituciones gracias eskerrik asko

que si no era una cuestión de una carrera en la que se coloque primero en la foto ni el partido socialista ni el partido popular ni el partido nacionalista ni mucho menos podemos

hombre sí que es cierto que el copyright del registro de los lobbys no lo tienen ustedes porque es que existe

y que ha hablado de este tema y que se ha remitido al congreso de los diputados donde ustedes esta iniciativa procede de allí o sea la que usted me trae aquí es hija de la presentada en el congreso

en ninguno de esos aspectos ni quiero un cheque en blanco ni se lo pienso pedir he funcionado en política mucho tiempo he representado en distintos ámbitos de la política

que conversemos verdad que contrastemos opiniones y que si es posible lleguemos a acuerdos que favorezcan

para eso estamos aquí para eso yo he decidido que desde mi ámbito profesional vengo a la política y sí que me gustaría que cuando salga de este ámbito cuando decida que mi compromiso con la gestión de lo público termine tenga mi reingreso en mi ámbito profesional

por eso esa matización que hacíamos verdad con respecto al tema de las leyes de incompatibilidades en cargos públicos

partidos que apoyamos en este momento al gobierno vasco está usted haciendo no sé qué historias ha hecho el señor

que hay que impulsar aquellas normas de las que este parlamento ha dotado a un ejecutivo creo que eso no es malo

es que se le diga que sigan adoptando yo no he dicho ni he prejuzgado ni se prejuzga la iniciativa ni que sean buenas ni que sean malas ni que esté haciendo una loa

que más allá de las medidas en transparencia que pueda adoptar esta cámara que será en la ley de transparencia en la que yo creo que sí que conseguiremos llegar a un acuerdo me ha dado una sensación también un poco quejosa la intervención del señor latxaga

y a conseguiremos entre todos llegar a un acuerdo porque yo creo que lo que es

y hemos de ser capaces porque en otros parlamentos el vizcaíno lo hizo hace poco y lo hizo además también con el consenso de todas las fuerzas políticas

y seguramente la comunidad autónoma también la pueda tener pero no creo que eso sea óbice para decir que el gobierno vasco debe seguir impulsando cualquier medida que avance

que son cosas o cuestiones que desde aquí creemos que son necesarias y que eso desde luego

una enmienda transaccional más allá de que ha aceptado el proponente que se vote por puntos y yo siempre soy de las personas prácticas en las que considera que es mejor sacar algo que nada más vale el cincuenta que

creo que tenemos que ser capaces y lo veremos también en la siguiente iniciativa que vamos a tratar de dejar pelos en la gatera para llegar a un objetivo común que al final no deja de ser avanzar en medidas que se nos están reclamando de una forma muy firme por los ciudadanos

los nuevos actores que estén en este momento en la misma dirección eskerrik asko castelo andrea euzko abertzaleak latxaga jauna zurea da hitza

la primera a la señora castelo no estoy quejoso estoy de acuerdo prácticamente en lo que ha dicho usted pero con casi todo lo que ha dicho usted pero no estoy quejoso yo creo que lo es sí que creo que es

y recordar un poco de dónde venimos creo que se ha sido

con el devenir de este proyecto de ley yo creo que el proyecto de ley tenía un fin

para el verano de este año y no ha sido posible yo creo que por un montón de argucias

simplemente y no es quejarse pero bueno es constatar para mí una realidad

gobernu honek zerbait ona egiten ari dela aitortzea seguramente se podrá hacer más seguramente se podrá hacer mejor y seguramente se puede hacer por duplicado pero tanto les cuesta admitir que este gobierno hace algo bien tanto les cuesta admitir que el compromiso del lehendakari urkullu y del consejero erkoreka de alguna forma en esta materia en esta materia concretamente es firme

de ahí vienen las reticencias a apoyar la transaccional y a dibujar un escenario

euskadi no es valencia y por mucho que algunos se empeñen en equipararlos los ciudadanos vascos lo saben ha pasado de estar a punto de firmar la transaccional señora pinedo a una suerte de

con el jaccuse tirando al puchero una serie de nombres que poco o nada tienen que ver entre sí

de los que hacen autentica gala en nombre de la claridad

de las iniciativas parlamentarias y gubernamentales en esta materia se podía haber alargado mucho más pero por economía procesal me he detenido ahí y lo he hecho para dejar constancia de que existía vida

y es que de su iniciativa original y de algunas de las comparecencias de sus portavoces se desprende

que en honor a la verdad usted señor becerra

contigo con usted para que quede claro el mayor interesado en la existencia de gardena el mayor interesado en la existencia de gardena es este gobierno vasco

en cuanto a las denominadas puertas giratorias la ley uno barra dos mil catorce de este parlamento y el decreto que lo desarrolla regula los conflictos de intereses

no menos exigente que el presentado hace meses por las cortes de aragón entiendo que con el aval de su partido como proyecto con el pomposo nombre de

en cuanto al partido popular creo sinceramente como he dicho antes que han de actualizar su discurso y adecuarse un poco más a la realidad vasca con respecto a la pasada legislatura y la nonata ley de transparencia he de decir que algún grupo parlamentario como el suyo utilizó

reglamentarias a su disposición para anteponer sus intereses partidistas

parece que el partido popular va a apoyar la creación de una agencia vasca de transparencia gardena cosa que hasta ahora no era

de la transaccional así lo dice ustedes de alguna manera abogaban o han abogado siempre por un convenio con el consejo estatal

pronunciarnos porque pensamos que de alguna manera los ciudadanos vascos se merecen

una bueno pues un sistema prejudicial una

comunicar con el estado tiene su coste y nosotros no estamos por la labor

los valores de la transparencia y el buen gobierno es preciso como he dicho antes

que de alguna forma basada en la gobernanza pública en la buena gobernanza y para concluir quiero ser enormemente positivo y aprovechar otra vez

el buen ambiente que se ha creado hoy en torno a esta ley de transparencia para

a un trabajo que sea y nos vemos eskerrik asko

bai eskerrik asko mahaiburu andrea la verdad es que qué empezar

en orden pero sí que empezar con algo que me ha llamado mucho la atención de la primera intervención tanto

en ningún momento de su intervención han dicho ni la palabra corrupción ni la palabra puerta giratoria ni nada parecido en su primera intervención a mí me llama la atención que cuando uno no dice ni siquiera verbaliza la palabra corrupción como si estuviéramos jugando al tabú

la persona proponente que viene aquí y nos dice que gracias a ellos vamos a hablar de corrupción y de transparencia firme con ellos pero bueno eso es un pequeño detalle de los discursos que hemos escuchado hoy señor latxaga latxaga jauna

tampoco nos vamos a tapar los ojos señor latxaga o es que no existe el caso de miguel o es que no hay un problema en carranza o es que esas cosas son solo apuntes en un lado de un periódico que no interesan a nadie son problemas o es que no pasó nada en la o es que no pasó nada

que se traían por diferentes grupos no pasaba nada hombre tampoco vamos

sea perfectos tampoco valencia no seremos pero perfectos la arcadia prometida euskadi no es señor latxaga no es lamentablemente no es

la verdad que yo no quería entrar a estos términos pensaba que íbamos a quedarnos un poco

del buen rollo podríamos decir como ha dicho antes algún miembro pero la verdad

si no hemos llegado a un acuerdo ha sido postureo quizás no hemos llegado a un acuerdo porque algunos nos hemos mantenido firmes en algunos de los principios que defendíamos y no hemos

a obviarlos en esa ley porque creíamos que era una ley fundamental que tenía que cumplir sí o sí unos principios básicos a los que no estamos dispuestos a renunciar en ninguno de los momentos del debate bien

el acuerdo con nosotros es cierto yo estaba dispuesta a llegar a un acuerdo en esta pnl

como para llegar a un acuerdo pero claro uno pone la palabra corrupción

que con poner uso incorrecto de los recursos públicos es suficiente hombre si vamos a hablar de corrupción vamos a ponerle el nombre porque lo del uso incorrecto de usos públicos a mí me suena a otras cosas

iba a proceder a pedir la votación por puntos como ya ha hecho el señor sémper previamente en su intervención

tengo que decir aunque nos cueste señor sémper muy parecidas porque el tercer punto es que el gobierno siga haciendo

que el gobierno siga haciendo es que esta es la coletilla típica de todas las propuestas del partido nacionalista vasco que el gobierno siga haciendo

ningún sitio porque no avanzamos en la segunda parte yo se lo dije que pusiera exactamente para qué

me ha sacado así como por aquí pasa maría el tema del senador y me ha dicho para eso sí pero para los registros no

por lo tanto también participamos en esa votación se lo recuerdo yo le he dicho registro sí pero pongamos que queremos ese registro como vía de prevención de la corrupción verbalicemos las palabras pongámoslas las cosas tienen un nombre y eso se lo he dicho señor becerra

su propuesta a lo que ha acordado con los partidos que sustentan el gobierno

sí señor becerra usted aquí ponía cosas muy concretas que yo le dije que algunas de ellas en relación a la agencia de transparencia creía que era más oportuno que debatiéramos la propia ley y se lo digo de buenas

ningún problema pero luego hay otras cosas que usted pone aquí que se han quedado muy deslavadas porque usted ha hecho una primera intervención donde ha hecho el discurso de su pnl que no tiene absolutamente nada que ver con lo que ha acordado no hay nada de esas labur egingo dut propuestas concretas

no hay nada de esos diez años que usted ha dicho que estos señores y aquella señora le habrán dicho que verde les han segado no hay absolutamente nada de eso e insisto

dispuestas al acuerdo pero un acuerdo con ambición señor becerra eskerrik asko pinedo

gracias señor presidenta señora pinedo no se preocupe demasiado no pasa nada

mientras coincidamos y si no es en un acuerdo todos tranquilos permítame

creo que ya los argumentos están expuestos y puestos sobre la mesa y ahora parece que esto es ya más que uno que se gusta y va contando cosas oyendo

sí quiero salir al paso de algunas manifestaciones de algunas cosas que se han dicho porque me parece justo miren si nos queremos dotar de una ley de transparencia por qué es vamos al meollo de la cuestión

razonable que es bueno que es positivo que los ciudadanos tengan un acceso a la información de lo que sucede en sus instituciones de las medidas y de las decisiones que adoptamos los políticos porque mejora

mejorando el control de la actividad política y que eso además creemos que va a redundar en una recuperación de una confianza perdida que por diversos motivos y aquí cada uno ha contado su receta pero

que llegamos a un acuerdo de por qué ha sucedido a lo largo de estos últimos años

señor becerra con todos ustedes que creo que además de lo que dice la ley también nuestro propio comportamiento nuestra propia actitud en el desempeño de nuestra actividad política ayuda a la recuperación de la confianza de los ciudadanos y uno de esas actitudes es el de la humildad si me lo permite señor becerra creo que el ejercicio de la política como en cualquier otro aspecto de la vida pero la política especialmente con humildad ayuda a la recuperación

humildad que no se expresa o que no se demuestra cuando uno dice yo he venido sale el sol falta de humildad pero no pasa nada ya iremos aterrizando y también una falta de humildad existe

es esto que yo defiendo o los matices automáticamente convierten al que matiza

acusando al partido popular de que tenemos cierto complejo de venir a decir complejo de culpabilidad en torno a las puertas giratorias que no se referirá desde luego a ninguno de los miembros de esta cámara mire

asuntos probablemente de los más relevantes pero también de los más delicados

como le he dicho antes pero también con rigor no podemos convertir o condenar a la muerte civil a alguien que se dedica a la política

no podemos hacerlo no vale porque estaremos vetando la posibilidad de que gente capaz gente con buenas ideas y gentes con vocación de servicio público entre en política

encima luego cuando dejas el ejercicio de la política no puedes desarrollar ninguna actividad profesional pues oiga hemos hecho un pan con unas tortas y de esto creemos que podemos hablar con serenidad

claridad de que tiene cierto complejo si entran ustedes en este debate a debatir de esta manera bienvenidos serán porque lo otro será anclarse en una posición probablemente ventajista ergo quién se puede dedicar a la política el que cuando deje la política puede volver a su plaza de profesor universitario por ejemplo en la complutense de madrid qué estamos permitiendo que solo se puedan dedicar a la política los profesores de la universidad de la complutense de madrid y digo la universidad de la complutense de madrid como podría haber dicho otra seguro que usted me entiende quiero decir hablemos con rigor

legislar correctamente para acabar con los errores que sin duda ha habido y acabar con ellas y reformar

le reconozco que ante este tipo de manifestaciones tengo que saltar

duda sobre el apego a la realidad vasca del partido popular cuando ha dicho literalmente que

me revuelva porque nadie tiene el patrimonio de la adecuación o del entendimiento del pulso real de la realidad vasca usted tiene la suya a veces acertada otras equivocada a veces compartiremos otras no

pero le recuerdo una cosa a lo mejor usted no conoció la tramitación de esta ley nosotros no enmendamos en ningún momento la creación de una agencia vasca para este tema

de hecho de las doscientos cincuenta enmiendas que presentamos ni una cuestionaba

ni una de las más de doscientos cincuenta léaselas le animo que se anime a que lo lea porque también eso ayuda a la recuperación de la confianza es decir conoce los temas porque los ciudadanos que nos puedan estar escuchando si ve que un político

seguro que no con voluntad señor latxaga sino equivocadamente afirma cosas que no se adecua a la realidad pues dirá podría haber estudiado más este señor no

intervengo en defensa de la primera propuesta que los socialistas vascos presentamos en esta legislatura

que vamos con tres va a ser suficiente porque lo único que se está pidiendo aquí es que se recupere la ponencia para la

a fin de que elabore las directrices y objetivos mínimos que se deben incluir en los planes integrales de recuperación de estas comarcas entonces cuando reflexionaba yo en casa cómo afrontar la intervención

soy de sestao que me llevaron allí con seis meses tengo cuarenta y siete y no me he movido del pueblo quiero decir la comarca la conozco y lo que ha sido su historia desde el esplendor de las fábricas

manifestaciones de trabajadores el problema del paro en las familias y la dificultades por la que está pasando toda la comarca las conozco muy bien y en primera persona entonces claro cuando me tenía que enfrentar a esto decía bueno qué hago

el diario de sesiones del parlamento para ver cómo fue el origen de esta iniciativa verdad y vi que en aquellas intervenciones que hicieron todos los grupos se dieron datos evoluciones históricas opiniones formas de ver las cosas y

luego dije bueno pues voy a mirar un poco a qué a dedicado el año la ponencia y he visto un poco los trabajos por encima que se han ido desarrollando un año largo de trabajo que ha dado lugar a que comparezcan bueno a mucha documentación y en la que han comparecido

de instituciones han comparecido veinte representantes diecisiete de asociaciones y cuatro expertos en diferentes materias económicas y urbanísticas

cuál es tu propuesta clarita y concisa para la margen izquierda pero había algo dentro que me decía que no que yo no podía hacer esto siendo de la margen izquierda y habiendo vivido esto y

que me pusiera en el lugar de un ciudadano de esa comarca por eso yo me alegraba que ese fuera mi primer punto

bueno pensé que tampoco tendría mucho que convenceros porque como se había creado por unanimidad y habíais trabajado en una ponencia en una buena relación

pensé como un ciudadano de la margen izquierda en el que le han dicho oiga en el parlamento se han puesto las pilas y han empezado a ver qué pueden hacer por la comarca de ezkerraldea de meatzaldea y oarsoaldea llevan un año trabajando

de la comarca y tal y ahora quieren concluir

cualquier vecino mío me diría perfecto vale pues venga ahora que se pongan las pilas

mucho tiempo esperando y en esa filosofía cuando me encontré con las enmiendas del resto de los grupos estuvimos hablando

que pudiera costar tanto llegar a un consenso hace escasos minutos hemos conseguido una transaccional

y nosotros y yo tengo claro y yo creo que no solamente claro yo sino también todos los alcaldes que

que los planes que han de ponerse en marcha y las directrices que demos y los objetivos que marquemos tienen o requieren del consenso y de la colaboración interinstitucional

vasco o bien sea el gobierno estatal por sí solos poner en marcha un plan

se han basado en la colaboración de todas las instituciones en objetivos concretos bueno en ese

es por la que hemos rebajado yo creo que también nuestras posiciones o hemos aceptado llegar a un acuerdo cuando se llega a un acuerdo no sé quién me lo decía antes en una propuesta hay que dejar pelos en la gatera es decir cuando uno quiere acercar posturas uno da un paso para adelante

hay que dejar algunas cuestiones debajo de la mesa qué hemos llegado a acordar después de tantas idas y venidas y correos

que vamos a dar la oportunidad a aquellos grupos que se incorporan

alguna comparecencia adicional a las cuarenta y uno que ya se han producido y que esta ponencia finalizará sus trabajos en un plazo de seis meses desde que se produzcan esas comparecencias y es una cosa clara

necesitamos que este parlamento apruebe unas directrices y unos objetivos mínimos para que en las comarcas de ezkerraldea meatzaldea y oarsoaldea podamos poner en marcha

y estable yo quiero entender y en ello me voy a quedar de momento que todo este ir y venir de propuestas ha venido motivado exclusivamente

y la pasión que han demostrado los parlamentarios que han tenido que intervenir en la redacción de la transaccional y espero
este reto siga despertando tanta pasión cuando estemos en el proceso de conclusiones para el desarrollo de nuestras comarcas muchas gracias eskerrik asko

coincidimos con la propuesta del partido socialista en cuanto a la exposición de motivos y también con la propuesta que la pasada legislatura euskal herria bildu presentó

a la ponencia parlamentaria coincidimos por la importancia que como decía la señora castelo tiene esta ponencia para extraer las guías esenciales para que las instituciones públicas vascas establezcan las directrices fundamentales para recuperar social y económicamente estas comarcas como son las de la margen izquierda

gráfica representan esta euskadi a dos velocidades que tenemos en este momento comarcas que además junto a otras que yo creo que también podríamos actualizarlo

de otras empresas de la comarca gráficamente representan el furgón de cola de esta euskadi comarcas además

en la ponencia en apenas metros de separación

de bilbao soportan diferencias en el producto interior bruto per cápita

aproximadamente en la margen derecha a veinticinco mil en la margen

seguramente señora castelo usted lo conocerá igual de bien que yo supone estar dieciséis puntos por debajo de la media de euskadi comarcas que además según

en esos mismos escasos metros de diferencia de la ría de bilbao estos y otros datos probablemente son los que se han visto

datos a los que hemos tenido acceso y en los que seguiremos trabajando y por eso mismo reafirmamos la importancia

este tema para nuestro grupo parlamentario pero también para el conjunto de la sociedad vasca porque las conclusiones y las directrices que marquen esta ponencia conseguirán o no depende del acierto de la ponencia acabar con la desigualdad en un espacio geográfico tan pequeño como el que representa nuestro país y también intolerable por otra parte y también

otro sitio hay que acabar y esta ponencia tiene que tener entre sus objetivos principales como decía acabar con la desigualdad

personal que marcan e influyen el desarrollo de poblaciones enteras de estas comarcas y en definitiva acabar o no

comarcas pero por todo ello en la enmienda a la totalidad que presentábamos y que ahora con la enmienda

pensábamos que el volumen de información y de comparecencias que había habido en la pasada legislatura necesitaba de un tiempo prudencial para poder analizarlo y para poder trabajarlo ponencias por otra parte que consideramos numerosas y valiosas y dada

estrella o la novedad de esta jornada que sí que se incorpora un nuevo grupo parlamentario y que no que no amanece con nosotros

en el parlamento vasco también queremos tener la oportunidad de estudiar de trabajar de compartir el trabajo realizado en la anterior

y además poder también solicitar como así recoge la enmienda la comparecencia de algunas personas y colectivos que pensamos que puedan ser interesantes para las conclusiones de las ponencias unas conclusiones que como decía deberán guiar la actuación de las instituciones vascas en estas comarcas

estamos representados en esta cámara deberemos trabajar mucho más allá de las fronteras

algunos y algunas como oposición y otras como gobierno y estoy hablando del congreso y de la comisión y de la unión europea para que las conclusiones que establezca esta ponencia y que las directrices que establezca esta ponencia puedan aplicarse de una forma mucho más eficaz y digo esto aquí hoy y también lo diré

aportaremos porque a nadie se le escapa el papel central que en algunas materias aún tiene el estado por ejemplo en la titularidad de terrenos en estas zonas

sin transferir y además tampoco se le escapa a nadie el papel que juega y jugará en la comisión y la unión europea en su conjunto a la hora de permitir o de limitar la intervención

a la ponencia parlamentaria que si dicha intervención pública aunque no solo la recuperación y la industrialización de estas comarcas no será posible por eso por la importancia que la dábamos a esta ponencia también por la urgencia

reclamábamos en ese momento un tiempo que pensábamos prudencial para poder trabajar pero señora castelo lo siento

que se ha puesto en su intervención hemos llegado a este acuerdo hemos llegado felizmente a este acuerdo pero no aceptamos esa argumentación que hacía que nuestras enmiendas iban a entorpecer o iban a atrasar el trabajo parlamentario creo que

en los años ochenta para hacer ver que algunos

tarde en este punto y una vez que hemos alcanzado el acuerdo creo que corresponde instarnos a todos los grupos parlamentarios a ponernos en marcha cuanto antes

de la ponencia mejor la semana que viene que en el mes de enero nuestra disposición aquí la dejamos hoy eskerrik asko

aho bateko erabaki eta akordio baten eskutik dator el siete de mayo de dos mil quince esta cámara aprobó también por unanimidad una proposición no de ley presentada por

que daba lugar a la creación de una ponencia parlamentaria destinada a analizar y proponer vías de resolución

y margen izquierda incluyendo en esta última o junto a esta última para no herir susceptibilidades

que expresaban cuatro ideas fundamentales que voy a repetir hoy

ya que al fin y al cabo es esta iniciativa la que estamos recuperando

a poner en valor en primer lugar constatábamos en aquel momento

que la gravedad de la situación de las comarcas objeto de atención en esta ponencia

al resto de comarcas de esta comunidad exigía una intervención activa y prioritaria en las mismas en segundo lugar se acordaba la creación de la propia ponencia con el objetivo literal de analizar con los agente industriales políticos sociales e institucionales

las posibles soluciones a la situación socio económica de estas comarcas en tercer lugar se encomendaba a esta ponencia

que habrán de contener sendos planes interinstitucionales para la regeneración

con lo que no solamente se confería a este órgano la potestad de estudiar la situación

la proposición de medidas de reactivación en forma de directrices y objetivos y se aceptaba además explícitamente y esto es muy importante la necesidad de dar salida a estas propuestas a través de la elaboración de sendos planes interinstitucionales de regeneración comarcal

a la declaración de estas comarcas como zonas desfavorecidas por la unión europea

económico y competitividad la materialización de las ayudas productivas que tal declaración autorizaba petición que el departamento llevaría a cabo más tarde a través del plan indartu y todo no va a ser buen rollo tengo que decir en opinión de este grupo con muy modestos resultados urriaren hamairuan iazko urriaren hamairuan ponentzia honek bere ibilbideari hasiera eman zion

cristina ruiz alderdi popularreko kidea jon azkue

akordio bat lortu dugu ponentzia hau guztion artean berraktibatzeko y creemos que era importante y por eso hemos insistido en la necesidad de hacer una serie de cambios sobre la proposición inicial creemos que era importante hacer esa serie de cambios para conseguir tres objetivos en primer lugar

una decisión compartida tal y como fue compartida el inicio de la ponencia en dos mil quince y para que tratáramos

con el que se ha desarrollado también los trabajos de la misma pensábamos que podía ser pudiera ser posible que dado que la

que existiera la necesidad de solicitar alguna comparecencia adicional incluso por parte de los grupos

a la cámara tenían derecho también a ser participes

era más limitado pero sí dejar su impronta y tratar de

de que invitaran a comparecer a las personas que estimaran oportunas desde luego no estamos hablando de una dilación o de una propuesta como al final

que hiciera o que atrasara sine die la culminación de los trabajos de esta ponencia

y hacer las cosas bien y con rigor a veces es mucho mejor que hacerlas deprisa y corriendo y por eso pensábamos que había que darle una pensada a la propuesta inicial

pues algunos pelos en la gatera al final hemos conseguido llegar a ese acuerdo

que estamos analizando o en otras pero igualdad no significa uniformidad

mayor atención y recursos por parte de las instituciones y lo tienen de manera inherente a su situación de necesidad en respuesta a una elemental actitud de solidaridad

se percibe o se multiplica de forma más acusada aún si como en el caso que nos ocupa estas comarcas hoy en situación de postración socioeconómica han sido en su momento las comarcas tractoras del resto del país durante mucho tiempo y si además fruto de esa tarea de tracción

un enorme sacrificio humano urbanístico y medioambiental una tercera razón para un esfuerzo específico hacia estas comarcas se basa en el hecho de que la razón de su situación se encuentre también en buena medida en un proceso de desindustrialización

que ha dado pie a una situación de debilidad estructural en el tejido productivo de estas áreas por tanto nos encontramos también y por todas estas razones ante una situación de deuda moral

a saldar sobre todo si realmente las conclusiones son fructíferas y realmente da pie a un trabajo que destine los recursos y las energías suficientes porque evidentemente no estamos ante una cuestión sencilla ezkerraldea eta oarsoaldearen egoera abiapuntua hartuta uste dugu

y nos hubiéramos perdido en un debate sobre las formas y los modos que pudiera que sean importantes que lo son

todos nosotros y nosotras tenemos que no es otro que avanzar en una ponencia que aborde la situación y las posibles soluciones de comarcas en situación económica y de paro

que requieren de la ayuda de todas y todos para que quienes lo pasan mal pues avancen conjuntamente con el resto de euskadi para que nadie se quede relegado

para la crisis económica que nos ha dejado exhaustos pero jamás rendidos ez naiz luzatuko sakoneko gaia luzerako ematen badu ere

de hecho la ponencia ha ido recibiendo en un ambiente que yo podría caracterizar de cordial y estaríamos en general todos de acuerdo a decenas de personas que tenían cosas importantes que contarnos

de la legislatura la ponencia disponía de una ingente documentación

va costar asimilar y digerir una vez acabada la legislatura

pareciendo lógico de toda lógica aprovechar el trabajo realizado en dos mil quince y dos mil dieciséis reactivando aquella ponencia

que no es el objetivo de mi intervención jamás lo es y lo verán a lo largo de la legislatura el gobierno vasco a través del programa indartu en su convocatoria del dos mil quince otorgó ayudas a ezkerraldea

ochenta y nueve millónes de euros de inversión en diez nuevos proyectos industriales creando un total de cuatrocientos veintiséis nuevos empleos

y en breves días supongo que tendremos noticias de ella es decir siendo la ponencia un instrumento muy importante que ha permitido y permitirá que sus señorías

y cuáles son los sueños y los deseos de sus gentes las administraciones desde los propios ayuntamientos de las comarcas las diputaciones forales

siguen trabajando porque son tan conscientes de la realidad que se vive en ezkerraldea

me hubiera dado pena no poder haber llegado a la unanimidad en la propuesta de retomar esta ponencia y los que me han precedido en la palabra lo saben

y como mi deseo es que la ponencia siga con todos sus trabajos y si somos capaces que yo creo que sí en el buen ambiente que la presidió la pasada legislatura

más allá de la satisfacción del esfuerzo hecho por todos para esta unanimidad aunque analizando muy brevemente la transacción que nosotros teníamos de eaj pnv

la diferencia de una quizás mayor concreción en número de posibles comparecencias y en plazos

pero no vamos a discutir si son diez o catorce

pero no era ni bueno ni lógico y va a salir una propuesta por unanimidad que dice lo que todos decíamos inicialmente por separado que se reanude la ponencia

la nueva presencia de elkarrekin podemos en la cámara y que todo ello se haga con relativa celeridad si eso es lo que todos queríamos hoy lo vamos a aprobar de manera unánime mientras de que la otra manera nos podían separar

matices que espero de verdad espero no marquen los futuros trabajos que los matices son eso rescoldos residuales que no deben hacernos abandonar el camino que nos hemos trazado para colaborar entre todos los grupos de esta cámara en aportar ideas y convicciones para cooperar en solucionar los problemas de ezkerraldea y oarsoldea

y ese ir tiene que ser con la voluntad de aportar y colaborar

que dijo no puede haber grandes dificultades donde abunda la buena voluntad

y eso yo se la supongo a todas y a todos los que participaran en esta ponencia y eso
con una clavícula solo cuando tenga las dos ya verán muchas gracias eskerrik asko tellería jauna

sí muchas gracias señora presidenta nosotros no hicimos enmienda porque estábamos de acuerdo con la propuesta inicial

entender cómo era casi imposible llegar a un acuerdo entre todos los grupos

yo voy a retomar las palabras del lehendakari cuando el otro día nos decía que el empleo es la mejor política social entre otras cosas porque esta es una frase muy del partido popular desde hace muchos años que cuando estamos hablando de la margen izquierda de la comarca de oarsoaldea o de la zona minera

de empleo y yo reconociendo los trabajos que se han hecho en la ponencia anterior

es verdad que han comparecido más de cuarenta personas pero yo echo en falta a los agentes sociales si

yo no he visto que los empresarios hayan comparecido y

tampoco hayan comparecido y entiendo que si todos estamos de acuerdo

de poder comparecer también quiero decir que y retomando las palabras del representante del partido nacionalista vasco esto de que lo importante nos llega sino que hay que ir a ver si vamos yendo yendo yendo y no llegamos nunca y me explico porque

todos los alcaldes de los ayuntamientos afectados al menos dos cuando no tres diputados forales de las dos diputaciones forales afectadas al menos dos consejeros del gobierno vasco y todos coinciden en lo mismo y al final lo que estamos pidiendo es que se haga un plan interinstitucional

vaya yendo ya con ese plan y ese borrador del plan

en esta ponencia digo para que tenga alguna utilidad ese borrador lo podamos tener y a la hora de hacer las conclusiones los grupos podamos aportar a esos borradores de planes interinstitucionales y al representante del partido nacionalista vasco

no es un buen ejemplo de actuación que estando en las fechas que estamos del dos mil dieciséis es decir acabando el año dos mil dieciséis

pues en fin sigan sin estar materializadas lo cual significa

y esto es responsabilidad del gobierno y yo sin más agradecerles a todos nosotros evidentemente colaboraremos en esta ponencia

en partidas contantes y sonantes en el presupuesto porque aquí todo el mundo se pone las medallas y lo que trabaje le preocupa la margen izquierda pero voy a recordar que solo nuestro grupo

que fueron rechazadas por esos grupos que tanto se preocupan de la margen izquierda eskerrik asko damborenea jauna erantzuteko txandan

no voy a dar contestación a las últimas palabras que ha dicho el señor antón damborenea cuando nos dice que algunos parece que nos preocupamos mucho por la margen izquierda a mí me gustaría que algunos en vez de preocuparse tanto harían algo más

desde donde gobiernan que seguramente nos hubiera ido muchísimo mejor a la margen izquierda desde hace

yo me debo estar explicando muy mal en esta primera intervención y ya intentaré luego revisar

yo no me he querido poner medallas en ningún momento con el tema de la margen izquierda

no es que lleguemos tarde nosotros es que llegan tarde ustedes o sea llegamos todos tarde a la situación

pero no era una cuestión de saber quién llega el primero o el último o quién ha tenido más o menos responsabilidad porque a esto le han intentado poner solución y ha habido planes

cámara ha iniciado un trabajo la legislatura pasada y que creía que era fundamental

y mi grupo acabara y acabara con una cosa concreta o sea o en un tiempo concreto es decir está bien hemos aceptado el tema de que igual es verdad hay mucha documentación se va a necesitar tiempo yo misma voy a necesitar tiempo para poder procesar toda la documentación que hay pero

hay que andarlo pero hay que llegar a la meta esa meta nosotros creíamos que tenía que quedar fijada que no podíamos volver a quedar en un tema indefinido de lo más pronto posible en

de acuerdo pues ha habido por un lado vamos a permitir nuevas comparecencias vamos a seguir en ese talante entusiasta activo positivo y cordial que han dicho los diferentes miembros que han intervenido en este asunto

y a agentes privados que tienen que intervenir en esta comarca

decir creo que hay una velocidad justa y adecuada y es la que tendremos

en este asunto y creo que es importante que seamos capaces de concluir y es verdad las comarcas necesitan una atención especial es verdad tiene que ser una decisión compartida y es verdad que lo importante es fijar unos plazos en los que podamos decir cuáles son los criterios y los objetivos mínimos

y esperamos no demostrarle una buena voluntad sino una excelente voluntad para llegar a un buen fin en lo que podamos ayudar o aportar para la mejora del futuro de las comarcas de la margen izquierda zona minera y oarsaldea eso sí perdónanos si en algún momento nuestra pasión hace que nos encendamos pero sí yo creo que vamos a ser capaces de llegar al final no solamente recorrer el camino sino llegar al final porque eso es al final lo importante

congratularme y agradeceros a todo el apoyo que va a recibir la iniciativa y desearnos a todos que seamos capaces de llegar

ciudadanos y ciudadanas que vivimos en estas comarcas eskerrik asko castelo anderea beste norbaitek hitza hartu nahi du

sin más y sencillamente verle saltar eman behin eta

el camino que hemos conseguido hacer hasta hoy y señalar

prudencial pero sin necesidad tampoco

como de los relatos yo creo que tanto hoy como luego en la comisión cada uno de nuestros grupos parlamentarios tendremos que explicar con la mayor de las sinceridades posibles el relato de lo que ha pasado el relato de la situación y

de estas comarcas para luego poder ver si somos capaces de llegar a un acuerdo

la posibilidad de que los acuerdos no necesariamente tengan que ocultar profundas diferencias de

y que ojalá y que nuestra disposición está ahí lleguemos a conclusiones positivas

para estas comarcas que en realidad es para los que tenemos que trabajar los grupos para solucionar la situación
dramática de las comarcas que hemos analizado y que los datos están encima de la mesa nada más eskerrik asko eskerrik asko martínez zatón jauna

baldintzak hobeak sortzen duen giro batean y una última cuestión

una cuestión que ha mencionado el señor damborenea usted mismo yo creo que cuando decía que no entendía muy bien las diferencias

pues usted se ha respondido cuando ha echado de menos diversas comparecencias

como de los dos sindicatos que no vinieron que en su momento estaban solicitadas y que por el final abrupto de la pasada legislatura no se pudieron llegar a materializar también por problemas de agenda

se hizo un volumen ingente de trabajo de documentación y de comparecencias pero todavía quedaban

la posibilidad de hacer alguna petición más y evidentemente mayor aún es esa necesidad en el caso de los grupos que se incorporan

y sabéis perfectamente lo que he dicho ha habido un momento en que los árboles no nos dejaban ver el bosque y hemos desbrozado el camino y perfecto me he quedado sorprendido por la envestida del señor damborenea que bueno

y entonces me ha venido sin más una frase a la cabeza

no se la tome directamente en su expresión sino en su simbología dijo schopenhauer creo que más lamarckiana que darwinista

que un toro no enviste porque tiene cuernos tiene cuernos porque quiere envestir muchas gracias eskerrik asko

zurea da hitza muchas gracias señora presidenta yo no le voy a discutir
ni de toros ni de cuernos que veo que conoce más la materia que yo yo lo que le quería recordar a usted es que ustedes gobiernan en el gobierno vasco en las diputaciones forales en los ayuntamientos y que si todos los grupos décimos que hace falta un plan interinstitucional
le repito a la señora consejera que se vaya poniendo las pilas nada más y muchas gracias eskerrik asko damborenea jauna

el partido popular vuelve a traer una iniciativa que preocupa a los ciudadanos la modificación del sistema y de la normativa de ayudas sociales

en un debate interesante y por el que mostró una preocupación en su discurso de investidura

como ya lo hemos hecho a lo largo de las últimas legislaturas como también lo hicieron los ciudadanos a través de cuarenta mil firmas presentadas en este parlamento

y no se admitió la toma en consideración de su iniciativa de la iniciativa legislativa popular posteriormente el partido popular se hizo eco de esa iniciativa

en consideración por lo tanto la voz de los ciudadanos fue silenciada y teniendo en cuenta que el debate sigue estando en la calle que el debate preocupa a los ciudadanos y teniendo en cuenta que este gobierno no ha hecho nada durante los últimos cuatro años volvemos a traer esta cuestión al parlamento vasco en esta primera iniciativa para debate en esta cámara

de la legislatura anterior negando abrir un debate sobre el sistema de protección en euskadi sobre el sistema de las ayudas sociales eso sí de la legislatura en el último año o más bien en la última mitad del año reconoció que podía haber problemas quizás

que proporcionaba el gobierno ante las preguntas del partido popular tres años negando la existencia de deficiencias en el sistema para

de los datos esos datos que mostraban que existían ciento treinta y tres millónes de euros de cobros indebidos

esos datos que evidenciaban que no se había llegado a la tasa de intermediación y al objetivo

y esas últimas declaraciones con las que nos sorprendía

o incluso el propio viceconsejero cuando señalaba que sus hijos

honek ez duela ezer egin berriro erabaki dugu proposamen hau aurkeztea queremos por tanto poner de manifiesto desde el grupo popular una vez más en esta cámara la inacción de este gobierno durante toda la pasada legislatura a la hora de abordar la cuestión de las ayudas sociales del sistema de protección

en un problema que está ya detectado que estaba ya detectado y que como digo

que rendir a la evidencia y ahí están todas las declaraciones a las que acabo de hacer referencia por eso creemos

no es momento de pactos señorías no es momento de estudios es el momento porque tenía que haber sido ya el momento de pasar a la acción

en la última comparecencia en la que hacía el balance de lanbide correspondiente a los años dos mil doce dos mil trece dos mil catorce dos mil quince

de la situación y más cuando el propio lehendakari nos dice que hay que reformar el sistema en su primera comparecencia en este parlamento por lo tanto

y cuando digo ya existía un diagnóstico claro de la situación en el sistema vasco de protección

que es muy clara va en consonancia con la demanda que hay en la calle va en consonancia con las

instar al gobierno vasco a que se presente una propuesta en los cuatro meses siguientes de modificación de la normativa de ayudas sociales

eficaz y eficiente desde luego es una herramienta imprescindible de cohesión social y de lucha contra la pobreza la justicia social y la solidaridad son principios desde luego que constituyen nuestra seña de identidad

con miles de ciudadanos vascos la preocupación por evitar situaciones abusivas de abusos de fraude por salvaguardar los derechos de los más débiles

corregir las múltiples deficiencias que presenta el sistema cuando tenemos una herramienta propia como es lanbide que ha sido una oportunidad a raíz

de empleo una herramienta propia para combatir el desempleo y desde luego para seguir en esa senda de la recuperación en la que nos ha colocado

de españa porque aquí el gobierno vasco no ha hecho nada en materia de empleo y a los hechos nos remitimos a los datos nos remitimos sobre todo con el fracaso constatado

que quieren un sistema más eficaz más justo más solidario que salvaguarde como decía los derechos de los más débiles

esas situaciones abusivas que también reconocía el señor lehendakari no sé si en el ímpetu de una mañana

que a veces le acompaña de pragmatismo pero que luego no ha ido acompañado

cuando el mismo reconocía que había situaciones abusivas y que la mejor prueba de justicia social y muestra de justicia social es precisamente combatir

injusticias esas situaciones abusivas y esas situaciones de fraude la existencia de abusos y de fraude por lo tanto para nosotros es la mayor muestra de insolidaridad que puede haber por ello es obligación los mecanismos necesarios para atajarlos reforzar los mecanismos de solidaridad

y que se quedan fuera como pueden ser aquellas personas que tienen una vivienda habitual pero que tienen un pequeño patrimonio como un pequeño trastero y actualmente no están en el sistema y se quedan fuera

desde luego una oportunidad a aquellas personas que están recibiendo ayudas sociales

que no queremos que se cronifiquen que también como decía el lehendakari no pueden estar condenadas estar en el sistema de protección decía todas estas cosa a lo largo de la pasada legislatura en las reiteradas preguntas interpelaciones que les hicimos

no han llegado a las soluciones y desde luego ahora cuando volvemos a presentar esta iniciativa nos vuelven a

y de estudios cuando desde luego la situación está muy clara cuál es la que es es el momento de conectar definitivamente

es el momento de que el sistema no solo tenga puerta de entrada sino también puerta de salida y es el momento desde luego de arbitrar las medidas

poner en marcha los convenios de inclusión esos itinerarios personales personalizados formativos para que la activación para el empleo sea una

sino del resto de europa representa el sistema el gasto

el cuarenta por ciento de las rentas mínimas de inserción de toda españa la mitad del presupuesto del departamento de empleo asuntos sociales entonces vivienda ahora empleo y asuntos sociales tras el reparto que ustedes han hecho con el partido

competencias desgajándose vivienda digo el sistema representa ese cuarenta por ciento de las rentas mínimas de inserción de toda españa en gasto

en los últimos presupuestos dos mil quince dos mil dieciséis que por cierto hay que recordar que la cantidad presupuestada inicialmente al configurarse esas ayudas como derecho subjetivo

de euros llegando a quinientos millónes de euros ese es el presupuesto la mitad del presupuesto más de la mitad del presupuesto del departamento

que es hora de asumir responsabilidades era hora de haber asumido responsabilidades y desde luego de haber velado porque los recursos se gestionen de una forma

que las ayudas lleguen a las personas que realmente lo necesitan y voy acabando haciendo una referencia a aquella comparecencia del trece de mayo

toña que sustituyó al señor aburto

qué hacía este gobierno cuando ve que las empresas pasan de lanbide qué hace un gobierno que tiene las competencias en lanbide claro ya sabemos que os obstaculizaron las transferencias de las políticas activas de empleo

gobierno vasco y que esa transferencia supuso un retraso pero ustedes han tenido cuatro años y en esos cuatro años no han hecho nada en esta cuestión decían que ambicionaban mejoras cualitativas nos decía el señor toña

que en los próximos días finalizarían sus reflexiones y elevarían al consejero que ha sido sustituido las recomendaciones técnicas que estimaron oportunas incluso nos decía el señor consejero que tenía un borrador encima de la mesa pero que como estaba ultimándose que todavía no nos lo podía proporcionar pero que la comisión estaba ultimando esos trabajos incluso nos decía que había tenido quince reuniones

nos llegan hoy hablando de un pacto hablando de la necesidad de optimizar todos los aspectos que tienen que ver con el sistema yo creo que más que optimizar

con el discurso del lehendakari salvo que sea un discurso de reformar el sistema en su primera comparecencia en la comparecencia de investidura en este pleno hablan de que se realice un diagnóstico yo creo que como decía el diagnóstico ya lo tenemos de sobra hablan de que se haga un informe por parte de una comisión técnica en cinco meses

lo tenía encima de la mesa a falta de los últimos retoques y creo señorías sencillamente que este acuerdo es una burla a este parlamento y a los miles de ciudadanos vascos que consideran que esta es una cuestión

problema que hay que abordar y que desde luego los responsables públicos tenemos que abordar

en sus responsabilidades de gobierno también porque así lo han querido los ciudadanos y digo esto porque

nos decía que el objetivo en esta legislatura era el tránsito hacia la empleabilidad

con una tasa de intermediación del tres coma veintiuno por ciento cuando no se han cumplido los propios objetivos que el señor aburto fijaba en una primera comparecencia del cinco por ciento

lanbide se estaba comiendo la gestión solo de los expedientes desde luego no se ha debido de hacer muy bien la gestión de los expedientes cuando se han generado ciento treinta y tres millónes de euros

cómo no tenemos un diagnóstico cuando hemos tenido aquí múltiples debates de empleo

cuando hemos tenido el debate del plan estratégico de lanbide con propuestas de resolución con un trabajo importante por parte de los grupos con representación en esta cámara por lo tanto señorías creo que no es hora de más maniobras dilatorias que no es hora de parchear y este acuerdo desde luego

en un asunto desde luego que ya tenía que haber tenido unas propuestas concretas de reforma de subsanar las múltiples deficiencias detectadas pero señorías hoy ustedes todos ustedes suscriben un acuerdo

de dejar solo al partido popular como han hecho en múltiples ocasiones a lo largo de la pasada legislatura pero no dejan solo al partido popular

a esos miles de vascos que ya trajeron aquí la pasada legislatura una iniciativa exigiendo medidas concretas exigiendo medidas concretas porque ustedes no adoptaron en su momento y que lamentablemente hoy con este acuerdo

aldatu nahi dugu hiritar ororen eskubideak bermatu ahal izateko comienza la proposición no de ley del grupo popular vasco hablando de solidaridad y justicia y es precisamente por justicia y solidaridad por lo que entendemos que es fundamental hacer una reforma de la renta de garantía de ingresos

aunque no parece que les interese en fundamentalmente tres aspectos lo primero es que consideramos que hace falta una reforma de la totalidad del sistema no solo de las prestaciones entendemos que esta reforma es necesaria

seguro que no coincidimos lo segundo es que precisamente en aras a la protección de las personas nuestra mirada como poder legislativo en euskadi

para ello tenemos la obligación de no utilizar esta herramienta como un arma arrojadiza para favorecer el racismo la xenofobia

en este país lo tercero pero no necesariamente en orden a la importancia que ocupa es que si hablamos de garantía de ingresos como un derecho ganado por y para la ciudadanía no nos podemos permitir sentarnos aquí a quitarle contenido

y eso ténganlo claro nosotras no hemos venido aquí a eso vertebrando el discurso de hoy en torno a estas tres ideas queremos desglosar las razones que nos llevaron a presentar una enmienda a la totalidad

en la proposición no de ley del partido popular se habla de ayudas sociales

pero también en coherencia con una altura mayor de miras queremos hablar de derecho y hablar de derecho implica hablar de prestación no sé si alguna de ustedes se preguntará por qué

decía eduardo galeano que a diferencia de la solidaridad que es horizontal y se ejerce de igual a igual

humilla a quien la recibe y jamás altera ni un poquito las relaciones de poder nosotras entendemos en el acceso a un derecho subjetivo no cabe hablar de caridad como no cabe hacerlo de ayuda

porque tal y como reza el artículo uno en la propia ley de garantía de ingresos esta

y en su marco el derecho a las prestaciones económicas y a los instrumentos orientados a prevenir el riesgo de exclusión a paliar situaciones de exclusión personal social y laboral

sociales o económicos suficientes para el ejercicio efectivo de los derechos sociales de la ciudadanía es decir facilitar la inclusión de quienes carezcan de recursos no pasa por ayudarles pasa por poner herramientas que son recursos de todas y todos a su disposición

garanticen el ejercicio efectivo de su derecho para poder garantizar ese derecho y poder ser coherentes con el fin de la propia normativa es indispensable apostar por que el acceso esté claro

pero también en la práctica a la totalidad de la ciudadanía que cumpla con esos requisitos por supuesto

pero entendemos que hablar de ayuda vacía de contenido el derecho

no existe lo segundo es que creemos firmemente que ustedes tienen una clara obsesión con perseguir el déficit de lanbide y coincidimos sin que sirva de precedente claro en que el sistema ha de ser eficiente e impecable pero en todos los ámbitos en lo que

de no haber nacido en el porcentaje de población que maneja la riqueza además

la persecución del fraude en todos los ámbitos aunque tal vez sea mucho esperar en todo caso y vuelvo al tema la pobreza no es algo que se elija y aunque creo que es difícil de pensar tal vez sea algo que podría pasarle a ustedes los datos lo dicen claro

en euskadi paraíso de las políticas sociales hay un índice de desigualdad que no para de crecer concretamente del veinte coma seis al veinticuatro coma seis entre dos mil ocho y dos mil catorce y veremos los datos que sigan llegando se estima que hay cerca de setenta mil hogares vascos que este año no podrán poner la calefacción y son nada menos

hay ya un dieciocho coma cinco por ciento de la población que no puede hacer frente a gastos imprevistos

pero eso no necesariamente pasa por crear más mecanismos de control que se sitúen por encima del derecho por encima de la protección y en definitiva por encima de las personas

en el fondo y en la forma no solo no contribuyen a la convivencia de una sociedad sana solidaria y justa sino que jalea a quienes lo están pasando mal contra quienes lo están pasando peor

señoras y señores del partido popular vale tanto el rédito político que esperan sacar de esto si mi permanencia en esta cámara pasa por ello

lo tercero es que consideramos que la reforma venidera de la renta de garantía de ingresos a de pasar inevitablemente por una mirada conjunta pero sobre todo que no hay que bromear con la ciudadanía

partiendo del estudio que ya se ha realizado y que se nombra en el texto consensuado que presentamos hoy entendemos que es prioritario buscar el tiempo y la forma más apropiados para reformar esta herramienta pero siempre y digo siempre en aras de dar más y mejor cobertura a toda la población

no en aras a juzgarla por ser culpable de no llegar a fin de mes o de no poder encontrar empleo en un mercado laboral cada vez más precarizado y más injusto donde solo ganan sus amigos de traje y corbata el empleo ha sido considerado la llave de acceso a derechos pero tenemos que abrir los ojos de una vez a una realidad evidente que es que el empleo ya no garantiza nada

tampoco garantiza derecho esto nos abre retos de reformas sobre muchas leyes muchas de las que han precarizado el empleo

eso está claro pero bueno volvamos al tema hay un hecho innegable

aunque pensemos que no funciona bien está sirviendo para paliar las consecuencias de reformas laborales

no quitemos las herramientas que de momento a pesar de que hay cosas que no funcionan está sirviendo para paliar las consecuencias más graves de todo eso en la mayor parte de la población en conclusión consideramos que ha de modificarse totalmente la proposición no de ley presentada por el grupo popular ya que si bien coincidimos en la necesidad de implementar un trabajo de reforma de la rgi

y mirando sobre todo por la protección de las personas con esta idea como motor hemos sido capaces hoy de llegar a un acuerdo en uno de los temas que para elkarrekin podemos es central y que además entendemos que es una cuestión de país entendemos que es necesario encontrar puntos en común porque como decía antes esto no va de sacar réditos políticos sino de mejorar la protección social

en este sentido es de justicia reconocer lo fundamental de los aportes de los otros grupos para que hoy presentemos una enmienda

que nos suponga un escenario de debate cómodo para todas queremos que se reforme el sistema garantizando su sostenibilidad y su viabilidad queremos también que esa reforma pase por un debate amplio en el que participen los agente sociales porque sin ellos este trabajo

esperamos que la transacción para lograr ese debate sosegado en plazos razonables y en un tema tan importante pueda ser la base para emprender un camino de largo recorrido que nos permita encontrar soluciones para cuestiones que preocupan a la ciudadanía

es imprescindible que permitamos la existencia de un debate de fondo

y una vuelta a todo aquello que no funciona sin perder de vista que lo que tiene que estar en el centro son las personas dicen en esta tierra ezina ekinez egina horregatik

era honetan azaltzen zuela el día de hoy va a marcar en euskadi y en el resto del estado español el inicio de una forma distinta de articular socialmente un país

van a empezar a obtener una respuesta solidaria de las instituciones y esto ha sido así porque euskadi ha asumido la marginación

sino de la sociedad y como tal su solución no puede ser patrimonio de nadie sino de responsabilidad de todos baina batzuetan hasiera horietako asmo eta konpromiso moral horiek

muchas gracias presidenta buenos días señorías hoy iniciamos esta

en el último pleno de la legislatura anterior el treinta de junio de este año mi grupo parlamentario los socialistas vascos

esta iniciativa se presente con la intención de buscar un verdadero consenso para consolidar y fortalecer nuestro sistema vasco de protección social

ocurrió en la legislatura anterior ustedes trajeron una iniciativa similar para ir calentando motores para las elecciones municipales del dos mil quince y volvieron a traerla en mayo del dos mil dieciséis antes de las elecciones

su iniciativa no fue silenciada fue rechazada tenemos que huir de una vez para siempre de plantear un debate falso en esta materia que parta de transmitir al ciudadano la existencia de un supuesto fraude generalizado que se atribuye a colectivo inmigrantes falsamente y además

de presentar iniciativas que no vayan en la línea de mejorar el sistema sino todo lo contrario de empeorarlo sin un estudio serio previo

el consenso y eso es lo que ha ocurrido hasta hoy con las dos propuestas anteriores presentadas por el partido popular ante esta cámara han pervertido el debate y han impedido un análisis riguroso lo que mi grupo parlamentario y el grupo nacionalista vasco hemos propuesto

de amplio consenso para consolidar la financiación necesaria para mantenerla y garantizar

del sistema de protección social existente en nuestra comunidad autónoma creo que ha llegado el momento para ello los socialistas vascos hemos manifestado siempre en la cámara que estamos a favor de mejorar nuestro sistema de protección social y lo seguimos manteniendo hoy en este pleno no hemos cambiado nuestra postura

creemos en el sistema de protección social de euskadi es cierto como dice la señora garrido que es un sistema de los más avanzados no solo en españa sino en el resto de europa pero que puede ser revisado para ser mejorado somos conscientes de que

se han puesto de manifiesto nuevas situaciones de necesidad no previstas antes de la crisis

que se han presentado y que por diferentes razones han quedado excluidas y creemos que hay que aplicar cuantos mecanismos de control sean precisos para que las ayudas lleguen solo a los que deben recibirlas y no a otros mejorando interconexiones de datos y colaboración entre instituciones potenciando mecanismos de inspección y control entre otros a quien le corresponde se quede sin ayuda pero que nadie se quede con un euro que no le corresponde nosotros estamos a favor de la lucha contra el fraude pero en toda su amplitud también contra el fraude fiscal contra la economía sumergida contra la corrupción y además también contra el fraude social que respecto a los fraudes que acabo de señalar representa un porcentaje muy pequeño no se elimina identificando la procedencia del defraudador o del timador sino de la voluntad

sea por vía fiscal o sea por vía de ayudas sociales

naturales de euskadi o del resto de españa hay que estar contra todos los fraudes sea de extranjeros o sea de un ertzaina como hemos conocido hace poco que una norma sufra cambios de inicial para adaptarse a nuevas situaciones o corregir deficiencias que se hayan detectado durante su aplicación es algo normal es un proceso habitual

dentro de nuestro ordenamiento jurídico y para conseguir mejorar

un debate profundo sereno y serio sobre nuestro modelo de protección social por eso consideramos importante y así lo apoyamos en el pleno de treinta de junio de este año que el gobierno elaborara

y que en la actualidad está llevando a cabo la comisión técnica adscrita al departamento de empleo y políticas sociales

llegado nuestro grupo el grupo socialista con los grupos nacionalista vasco con

marca un plazo de cinco meses para que el gobierno presente ante la comisión de empleo políticas sociales y juventud el resultado de este informe

dentro de este informe se establezca el mecanismo más adecuado para proceder al estudio del mismo en el mes siguiente dando participación en el proceso

relacionados con las ayudas sociales y sirviendo todo ello

para iniciar la revisión de la normativa reguladora de la protección social actualmente vigente ese sí que es un planteamiento serio y debemos intentar

consenso entre los diferentes grupos parlamentarios que debemos y defendemos nuestro modelo de protección social debemos volver a revisar nuestro sistema eliminando todos los fraudes y detectando el problema real

como en el momento de su retirada el objetivo de nuestra protección social es que cada vez haya menos personas que necesiten ayudas sociales

para llevarlo a cabo y además requiere políticas

caritativas de conciliación los socialistas vascos queremos que quien recibe esas ayudas vuelvan a tener la oportunidad para vivir con un salario

de trabajo proponemos consolidar el modelo y expulsar a los defraudadores del mismo e incorporar a quienes no disponen de liquidez

más allá de lo previsto y proponemos desarrollar la previsión de ofrecer oportunidades de formación y empleo a quienes se han quedado la crisis económica ha hecho aumentar las causas y posibilidades de caer en la exclusión social con el empleo ya no siempre se sale de la necesidad y la pobreza infantil tienen niveles preocupantes y superiores a los niveles de pobreza de los adultos

agradezco a los diferentes grupos que hoy han firmado con nosotros la enmienda transaccional que se va a aprobar previsiblemente en este pleno haber realizado una vez más

y sorprende que la señora garrido y el partido popular no haya realizado el más mínimo esfuerzo por buscar un acuerdo con el resto de grupos de la cámara ni una llamada ni un correo absolutamente nada eso me hace dudar de la verdadera intención perseguida con esta iniciativa si verdaderamente quieren una reforma seria señorías del pp súmense

voten a favor de la misma y trabajen con todos de verdad en esta dirección de lo contrario estarán demostrando que les importa un bledo las ayudas sociales y la mejora del sistema de protección social y en este intento de consenso

del grupo eh bildu el párrafo b del punto uno de la transacción inicial que habíamos presentado el partido socialista

en la que se hacía referencia a la necesidad de que el pacto social contemple también potenciar los mecanismos de control para evitar posibles abusos

adecuadamente la adecuación utilización de las ayudas solo espero

ustedes piensen sea que son buenos los mecanismos de control porque esos mecanismos de control son los que sirven para garantizar el equilibrio

a las personas de la necesidad de cobrar la

con el máximo consenso para consolidar y seguir mejorando nuestro sistema de protección social la enmienda transaccional que hoy firmamos incluye de una forma

más amplia y detallada de las propuestas recogidas

de otra forma mucho más completa por tanto tiene la oportunidad de sumarse a una iniciativa seria nuestro sistema de protección social todavía están a tiempo para ello háganlo de una vez y dejen de engañar a los ciudadanos con propuestas vacías

partxeak ipintzen egongo ginatekeelako por lo tanto

a fin de dar la mejor respuesta posible a las personas que peor lo están pasando trabajemos todos los grupos por mejorar el sistema de protección social que tenemos y que ha servido como instrumento de cohesión social consiguiendo una sociedad más cohesionada justa y solidaria un sistema

en su conjunto y no solo de la persona que la sufre creo que es importante recordarlo

de alguno de los grupos se desprende justo lo contrario un sistema que queremos seguir manteniendo en el futuro para las siguientes generaciones para lo cual

y realista no podemos ni debemos dejar a nadie atrás

ni en el futuro tenemos que conseguir entre todos y todas un modelo sostenible y duradero que garantice unas prestaciones a las personas que peor lo están pasando

a dichas ayudas o prestaciones como le gusta decir a la señora guanche horregatik aurkeztu genuen osoko zuzenketa alderdi sozialistarekin batera prest gaudelako

es otro de los aspectos a revisar cuando abordemos la normativa en su conjunto pero pedimos a los demás grupos que lo hagamos de forma rigurosa y seria sin señalar a determinados colectivos y menos por su origen por su procedencia y por supuesto sin caer en ninguna estigmatización

hace referencia al trabajo de la comisión técnica interinstitucional que deberá elaborar un estudio profundo y serio que permita identificar los aspectos a mejorar en la tramitación y gestión de la rgi incluidos también los mecanismos de control

con la renta de garantía de ingresos ha sido trabajado en una comisión técnica adscrita al departamento de empleo y políticas sociales como también han mencionado otras portavoces han participado representantes de los diferentes niveles de la administración pública competentes en la materia incluida eudel batzorde hau lanean egon da

horregatik jaurlaritzari eskatzen diogu txostena legebiltzarrera bidali dezala amaitu eta berehala porque creemos firmemente que el contenido de dicho informe debe servirnos de base para proceder a la revisión y mejora del sistema de protección social esperemos a tener dicho informe para continuar dando pasos para estudiar y valorar las propuestas que en el mismo se recogen

para la modificación de la normativa reguladora de la protección social egia esan erraza izan dela adostasun zabal bat

las formaciones de forma sosegada en mejorar la normativa actual busquemos los consensos necesarios para ello la mejor protección social posible para las personas que peor lo están pasando todo ello sin olvidarnos que hemos de garantizar la financiación y sostenibilidad
del sistema en su conjunto tanto para el momento actual como de cara al futuro besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

gracias señora presidenta brevemente a la señora guanche decirle que

sistema de la renta de garantía de ingresos y aquí también fuimos pioneros

finales de los ochenta principios de los noventa y aquí el sistema tiene múltiples deficiencias y falla en lo fundamental que es en la empleabilidad que para eso conectamos las prestaciones económicas las ayudas sociales y las pusimos en lanbide para conectarlas finalmente con la

sostenible y que se ponga como decía al servicio de la empleabilidad

sánchez nosotros desde el grupo popular traemos iniciativas que preocupan a los ciudadanos y visto el portazo que dio esta cámara la pasada legislatura a la ilp suscrita por cuarenta mil ciudadanos con firmas de cuarenta mil ciudadanos

cuando hemos tenido iniciativas concretas que han podido abrir los debates y ni se han tomado en consideración como ustedes hicieron con esa iniciativa silenciando la voz de miles de ciudadanos vascos ustedes cortaron de raíz el debate en esta cámara porque esa iniciativa si se hubiera tomado en consideración se hubiera podido enmendar

en todos los ámbitos social

ostentábamos la diputación foral de álava la recaudación por fraude mejoró considerablemente se duplicó respecto a las cifras anteriores tuvo una progresión a

cosa que hay que decir que ahora la tendencia es inversa con el partido nacionalista vasco al frente de la diputación foral de álava claro peor me lo pone porque dice que

que hablaba de arbitrar mecanismos para combatir las situaciones irregulares abusivas o de fraude que pueda haber que todos reconocemos que las hay y que además las conocemos también muchas de ellas por los medios de comunicación por lo tanto peor me lo pone quiero decir que ustedes encima han rebajado

expectativas iniciales berriro ere

respuesta que se le puede dar a las personas que perciben una ayuda social que entran en el sistema es que tengan una puerta de salida

la percepción de ayudas sociales con la empleabilidad para eso hicimos la reforma del año dos mil once en la que expresamente pactamos con el partido socialista

también se incrementaron los controles porque las revisiones hay que recordar que eran anuales pusimos revisiones trimestrales pusimos también una previsión para que los preceptores de ayudas sociales realizaran también trabajos en beneficio de la comunidad

previsiones que ustedes no modificaron esa es la mejor política social desde luego para el partido popular es el empleo bueno algo que también nos decía el lehendakari que era la retahíla que utilizaba

porque lanbide y el fin de lanbide si usted se repasa la ley correspondiente en su artículo dos habla claramente de que el fin de lanbide tiene que ser la empleabilidad de las personas desocupadas y de las personas que están percibiendo ayudas sociales

la cuestión creo que sinceramente es una burla a los miles de ciudadanos que esperan ya soluciones que esperaban ya soluciones la pasada legislatura y desde luego no es el momento de las dilaciones

el pacto en política social existen desde hace muchos años en el país vasco más de veinte años

y el objetivo es poner definitivamente el sistema a favor de la empleabilidad y voy acabando señora presidenta

algunos de los términos además que ustedes utilizan en su enmienda de transacción hablando de optimizar cuando el señor lehendakari hablaba de reformar o sea su discurso fue absolutamente hueco por tanto el discurso de investidura del lehendakari que ustedes ahora han rebajado sustancialmente bien es una broma que nos hablen de cinco meses

el señor toña le podía haber pasado el borrador que me decía a mí que tenía en la comisión pero que a falta de los últimos detalles no nos lo proporcionaba y que ya había habido quince reuniones yo creo que por lo menos podía haber tenido la diferencia el señor toña de haberle pasado ese
borrador amaitu mesedez garrido andrea cinco meses para terminar un borrador cuando está el diagnóstico realizado

cuándo las soluciones señorías desde luego estamos ante un gobierno que sigue sin proponer medidas concretas para subsanar las múltiples deficiencias que tiene lanbide desde luego conectar definitivamente la percepción de las ayudas sociales con el empleo que se lo encomienda la ley la ley de lanbide que es desde luego

quiero empezar recordando que ayer fue el cumpleaños de lanbide cinco años desde que

ayer en las puertas de lanbide de varios sitios había manifestaciones de colectivos sociales porque todavía hoy cinco años después hay cosas que no funcionan y señora garrido yo no he dicho

en el fondo de por qué consideramos que las cosas no funcionan y por supuesto en las formas de cómo solucionarlas no considero que esto de llegar a un acuerdo con todos las

porque además creo que ustedes son expertas en hacer esto y ahí lo dejo no es una cuestión de gustos

que regula la renta de garantía de ingresos que regula el sistema vasco de garantía de ingresos en la legislación habla de ayudas para referirse aquellas que son las de emergencia social

hablaba de prestación además de que me gusta no lo voy a negar además de esto

esa palabra señora garrido pero optimizar en un sentido de mejora

apostamos también por un diagnóstico sí porque entendemos que hay que aprovechar ese trabajo de expertos que yo no voy a entrar en por qué si el señor toña lo tenía dentro del cajón o fuera y ahora se ha perdido o no

de lo que ya está hecho y partiendo de eso podremos buscar una reforma hablando tranquilamente no buscando sacar rédito político de esta reforma en cualquiera de los casos yo sí que veo claro

luego ya sobre cómo quede la rgi pues ya

en cualquier caso por qué eliminar el párrafo y tengo que apuntillar esto de que fue

planteamos la eliminación de ese párrafo porque consideramos que vincular el discurso

es obviar que en el sistema hoy por hoy existen medidas de control son medidas de control que yo conozco porque he acompañado a muchas personas

medidas de control como revisión semestral de los movimientos bancarios como control de entradas y salidas del país como control

tener suspendida la prestación por no hacer un uso responsable de sus recursos son medidas que fiscalizan la vida de las personas y que las tutelan como si estar en situación de pobreza estuviese incapacitado

que suponen suspensiones que no siempre son justas que no siempre atienden a la humanidad ni desde luego a las causas que están viviendo las personas perceptoras son suspensiones muchas veces injustificadas y que no siempre

en ese sentido y además hablando de que el fraude está por debajo del uno por ciento entendemos que hay otras cosas dentro del sistema que no funciona que hay que modificar otras cosas como por ejemplo que no se invierta en que haya personal suficiente para dar información sobre la rgi

puedan entregar su documentación esto vulnera derechos de la ciudadanía derechos que son

cuando está mal utilizada beraz berriz ere

imanol zuberoren hitzak ekarriko ditut berriro ona imanol zuberok esaten zuen que jetas hay en todos los sitios

y en los grupos políticos y en las sociedades gastronómicas en todos los sitios

mire señora garrido usted ha presentado una iniciativa prácticamente igual

cualquiera cualquier ciudadano coge su exposición ese día ha clavado prácticamente hoy la misma exactamente lo mismo que dijo el treinta de junio de este año

literal no ha hecho usted mucho esfuerzo por cambiar absolutamente nada

han pervertido este debate y lo saben perfectamente lo mejor que hubo en esta materia en la anterior legislatura es que todos los grupos parlamentarios tuvimos un consenso para no a tentaciones electoralistas como hicieron ustedes la legislatura anterior y espero que en esta legislatura siga existiendo ese consenso

de cuáles son las realidades actuales en este momento de ver los cambios que se han producido con la crisis económica que se ha sufrido todos estos años y de ese debate serio

y del trabajo que con posterioridad se tiene que efectuar aquí salgan las medidas que se tengan que adoptar o las modificaciones mejores conseguir una mejora de nuestro sistema de protección social y les vuelvo a decir es que hoy han hecho exactamente lo mismo otra vez también ustedes no han llamado a nadie no han intentado acercarse a ningún grupo han venido aquí y han preguntado habéis llegado a algún acuerdo o algo

porque quería venir aquí el pp solo todo el mundo contra nosotros exactamente igual que la legislatura anterior no se trata de eso

todos de una forma con consenso viendo y estudiando por dónde hacer las mejoras para conseguir esa reforma de la mejor manera posible para todos los ciudadanos y todas las ciudadanas vascas pero sin mayores tonterías y sin

hasta ahora en esta materia desde luego los socialistas hemos participado desde hace veinticinco años en la construcción del modelo de protección que tenemos

un nuevo derecho el de la inserción laboral de los perceptores pero lo referente a la inserción laboral todavía no se ha desarrollado el pp pervirtió el debate de las ayudas en la anterior legislatura el pnv esquivó su responsabilidad de revisar el modelo en esta última

hagámoslo de una forma serena de una forma seria y con el mayor consenso posible yo les invito desde luego a ustedes a sumarse

de partidos políticos de esta cámara para trabajar en esa línea todos hemos hecho un esfuerzo hoy para conseguir ese consenso

al que yo me estoy refiriendo y que no aparezca la mención de los mecanismos de control que sí venía en la primera

que podíamos querernos centrar solo en esos mecanismos de control y distorsionar un poco cual es el debate y la necesidad de corrección del sistema de protección social para mejorarlo

pero puede ser mejorado y en eso tenemos que trabajar todos les invito a que se sumen de una vez

una vez más el raca raca de la inacción de este gobierno cuatro años pasados sin hacer absolutamente nada todo está mal

nada de nada todo mal no hay ni una sola luz para usted y todo es crítica se lo han dicho se la ha dicho la señora sánchez ha hecho exactamente el mismo discurso que el día treinta de junio

por medio ha habido las elecciones al parlamento vasco y la ciudadanía esa que usted dice que este parlamento se silencia se pronuncióy precisamente avaló con sus votos la labor

pequeño detalle que se le ha olvidado a usted mire trayendo esta iniciativa aquí

aquí dice y repite y reitera que están mal en la normativa que esos fraudes que dice que existen lo que tiene que hacer es votar a favor de la iniciativa hacerlo de forma tranquila

tenemos ese informe que hemos dicho que creemos que es una muy buena base

ese diagnóstico de cuál es la situación y qué es todo aquello que pueda ser mejorado porque evidentemente todos los grupos estamos a favor de poder mejorar

los controles pero como también bien le han dicho usted como ha pervertido el debate en esta cuestión pero no hoy lo viene haciendo desde la legislatura anterior

a veces hay que dejarse cuestiones fuera del acuerdo pero

ustedes intentan solamente unir el fraude a los perceptores de rgi y en eso nosotros tampoco estamos de acuerdo y por eso no tuvimos problema

aunque cuando se habla de una mejora de la normativa los controles también están dentro de esa normativa por lo tanto lo que les invitamos sinceramente es a que se unan y voten a favor de esta iniciativa porque si de verdad quieren mejorar lo que tienen que hacer es votar a favor y no quedarse aquí ustedes solos hablando de que si

ocasiones que este debate se iba a retomar que se iba a hacer pero que había que hacerlo fuera de periodos electorales
se lo dijimos y se lo volvemos a repetir y ahora tiene el momento de ver si esa voluntad suya es tan clara eskerrik asko arregi